hautaketa prozesuetan eta berriz diseinatu beharko dira por tanto el objetivo específico de este proyecto de ley de cuerpos y escalas es avanzar en definir un modelo de función pública basado en conocimientos funcionales

no solo eso sino que se pretende resolver la complejidad jurídica existente en la actualidad en los procesos de acceso al empleo público en esta ley

que a su vez se clasifican en generales y especiales según el carácter homogéneo de sus funciones

acreditados en los procesos selectivos asimismo se crean las escalas necesarias dentro de los cuerpos de modo que se agrupen funciones que puedan ser desempeñadas por profesionales con titulaciones de diversos campos de estudio en este sentido

central superando el modelo vigente que implica acceder al empleo público con una titulación concreta y será a través de las relaciones de puestos de trabajo cómo se concreten los cuerpos y escalas para la provisión de los puestos de trabajo es decir

será en estas relaciones de puestos de trabajo donde se determine la escala preferente

en este sentido las relaciones de puestos de trabajo sin duda adquieren un papel fundamental como herramienta básica en la ordenación y organización de la administración

en resumen esta ley es absolutamente necesaria porque dotará de mayor seguridad jurídica

y facilitará el desarrollo de futuras ofertas de trabajo dicho todo lo anterior

fundamental por la que la aprobación hoy de esta ley supone un salto cualitativo para la administración vasca en nuestra apuesta y compromiso en la búsqueda de fórmulas

disposiciones que tienen como principal objetivo el reconocimiento de la experiencia de las personas que llevan tiempo trabajando en nuestra administración como personal interino un colectivo que sin ninguna duda aporta una experiencia y un conocimiento

en cuanto a estos procesos excepcionales de consolidación que nos consta han sido objeto de debate en profundidad durante su recorrido parlamentario quisiera subrayar lo siguiente

la administración vasca fue la primera en proponer a este parlamento un proceso especial de acceso a la administración vasca

en el transcurso de la tramitación parlamentaria se ha eliminado la redacción inicial

referida a la consolidación por razón de seguridad jurídica como recordarán el contenido de esta disposición era similar

y que fue anulada por el tribunal constitucional en todo momento hemos manifestado nuestra voluntad de estudiar la posibilidad de dar un tratamiento diferente a las situaciones temporales prolongadas en la administración

por lo tanto se pretende dar cobertura o la cobertura necesaria para afrontar estos procesos de consolidación consolidación de empleo temporal con las debidas garantías jurídicas laburbilduz lege honek

muchas gracias señora presidenta miembros del gobierno señorías

bien se somete hoy a votación en este parlamento el proyecto de ley el

pero como todos sabemos señorías en realidad esta ley no va

concretamente la parte de los cuerpos y escalas ha estado siempre en un segundo plano y como todo el mundo sabe pues esta ley de lo que ha ido ha sido de la discusión sobre las medidas para

en una comunidad autónoma como la nuestra que tiene una de las tasas de temporalidad más altas de toda españa esto no es ningún secreto fue reconocido por el propio servicio jurídico

que ha citado la señora consejera sobre la ley de policía de euskadi he escuchado con mucho interés el discurso de la consejera y lo cierto es que esta ley en realidad pues como le decía lo que se hizo en su momento fue

un ardid una técnica oiga a poder ser más o menos legítima pero en fin lo que se hizo fue desgajar la parte de cuerpos y escalas de la ley de empleo público

dos disposiciones adicionales como todo el mundo sabe que lo que pretendían era poner proponer en este caso una solución a la situación que se vivía de insoportable interinidad de la administración pública vasca qué es lo que ha venido sucediendo

declaró inconstitucional una de las dos disposiciones adicionales es decir

de manera excepcional y por una sola vez que es lo que suelen decir estas disposiciones pero la segunda que era el concurso más restringido la declaró inconstitucional

de esta ley y mientras tanto qué es lo que ha sucedido pues como dijo el tribunal constitucional

que es algo que se está ahora mismo pues discutido también en las cortes en el congreso de los diputados y en el senado por tanto

que esté basado en esto en la funcionarialización pues lógicamente está sometido y supeditado

cuando vengamos a votar la próxima ley de empleo público no la ley vasca de empleo público que también incluye otra vez una serie de disposiciones

es mucho más profunda efectivamente tiene muchísimas otras medidas pero este debate que vamos a tener hoy aquí lo vamos a volver a repetir durante las comparecencias que se desarrollaron en el transcurso del análisis del proyecto de ley que envió el gobierno

para exponernos su opinión y lo cierto es que el gran problema el gran problema que esta ley se entiende que venía a solucionar que es la alta tasa de interinidad

todavía no ha sido analizado realmente cómo tiene que ser es decir todavía a día de hoy carecemos de un informe

profundidad que nos diga por qué hemos llegado a esta alta situación de interinidad por supuesto hay que buscar una solución

lo que sería muy deseable es que el gobierno hubiese emitido producido mira que se lo hemos pedido veces un informe un estudio de por qué

alta tasa de interinidad lo máximo que hemos conseguido es una explicación es el principio de identidad las cosas son como son la situación es la que es todos sabemos

para poder atajar un problema y sobre todo que no se vuelva a repetir que esa expresión

que llevan estas leyes de excepcionalmente y por una sola vez cuántas excepcionalmente y por una sola vez ha habido en las administraciones españolas un montón

analizar el problema realmente y ver por qué esto realmente

qué dictamen ha quedado y qué proyecto de ley va a acabar siendo votado y va a salir adelante pues bueno es un proyecto de ley que en lo principal del nombre en cuerpos y escalas

se establecen una serie de cuerpos y escalas la única enmienda que nosotros hemos salvado para el pleno de hoy que ya entendemos que no saldrá adelante porque los grupos del gobierno

no la aceptan en los términos era incluir la escala especial de los funcionarios de prisiones

qué saldrá adelante saldrá adelante un proyecto de ley que bueno pues bien podía haber ido conjuntamente con la ley de empleo público y saldrá adelante una disposición

pero no habilita para un concurso digamos excepcional y para solucionar realmente el problema para solucionar realmente este problema de las altísimas tasas de interinidad por tanto

porque el problema lo vamos a seguir teniendo igual estamos a expensas de ver cómo queda la legislación básica para poder acometer

y todavía no sabemos exactamente cómo puede quedar la situación esa es la situación que tenemos hoy día señorías nosotros no obstante somos conscientes

esta gravísima situación que viven las administraciones vascas por eso sí que hemos facilitado con los grupos del gobierno una enmienda transaccional de las disposiciones finales que permita que cuando la situación se aclare la situación legislativa se aclare

que el gobierno vasco sí que pueda eventualmente sí que se pueda en el seno de la comunidad autónoma establecer unos procesos en su momento

a lo que hemos contribuido porque no podemos dejar la situación en la que están a las miles de personas

aun así nuestro voto al conjunto de la ley va a ser negativo por qué va a ser negativo nosotros solo pedíamos una cosa solo pedíamos una cosa que además

la ley se llama de los cuerpos y de las escalas de la administración de la comunidad autónoma vasca si acabamos de asumir una competencia en prisiones lo lógico sería que los funcionarios de prisiones que es una escala es un cuerpo especial

en la comunidad autónoma vasca claro me pueden decir hombre es que crear un cuerpo adicional es que otra vez no sé cuántos oiga es que si tenemos cuerpos de matemáticos de estadísticos en fin no

si ya hemos sido capaces de diferenciar tanto en ciertos gremios hombre yo creo que los funcionarios de prisiones

una situación suficientemente específica como para que vean reconocido

que veremos a ver de qué manera se acaba reconduciendo esa situación porque ahora mismo los funcionarios de prisiones recién transferidos están en una tierra de nadie esa es la razón por la cual

la respuesta fue negativa por tanto el balance de esta ley pues es yo creo que es una ley que no ha conseguido ninguno de los objetivos que buscaba y que en realidad lo que se hace es una vez más

la verdadera solución al problema muchas gracias señora presidenta eskerrik asko gordillo jauna

por parte de nuestro grupo de nuestra coalición me gustaría dirigirme a la consejera porque cuando vino a presentar el proyecto de ley

nosotros desde luego trasladamos un deseo sin ningún tipo de complejos y es que esta ley

con los grupos parlamentarios porque sabíamos que atendía a cosas importantes de la que dependen miles de trabajadores y trabajadoras públicos lamentablemente el resultado final desde luego no nos satisface voy a explicar ahora las razones del por qué pero desde luego

lamentamos mucho el resultado es verdad que el objeto de la ley

a él era la regulación de los cuerpos y escalas también modificaciones relativas al acceso al empleo público

pero el debate fundamental que hemos tenido en esta ley lo ha dicho también el señor gordillo yo estoy de acuerdo es el que tiene que ver con las disposiciones

para entrarle al problema porque sabíamos todas y todos que no íbamos a solucionar el problema de la altísima interinidad de la altísima temporalidad que tiene nuestra comunidad autónoma

un problema de temporalidad que yo voy a reafirmarme en una tesis que venimos manteniendo nuestro grupo parlamentario no tiene tanto que ver con las leyes que por supuesto influyen pero tiene mucho que ver la situación de altísima temporalidad que tiene esta comunidad autónoma en el empleo público

yo además me reafirmo hoy en estas palabras después de escuchar a algunos de los expertos que han pasado por la comisión de instituciones

en relación tanto a esta ley como a la ley de empleo público que también está en trámite

en esta cámara pero partiendo de ese

el hecho de que esas disposiciones adicionales podían suponer un paso adelante que no iba a solucionar este gran problema pero un paso adelante

de muchas y muchos trabajadores que están en esta situación yo entiendo que el gobierno saque pecho afirmando hoy

que esto viene también a impulso de los sindicatos de los representantes de los trabajadores que estas disposiciones adicionales estaban incluidas en esta ley porque así se acordó con una parte de los sindicatos que eran dos disposiciones que ellos reclamaban para la ley de empleo público y que se incluyeron en esta ley porque supuestamente iba a venir antes e iba a ser más fácil de aprobar que la ley de empleo público finalmente la diferencia temporal no va a ser tanta ese es el primer elemento que desvirtúa un poco

la sentencia del tribunal constitucional sobre otra ley sobre una disposición muy similar a la disposición adicional segunda de esta ley que prácticamente la anulaba aunque en nuestra opinión eso no debería ser renuncia para seguir adelante con ella en cualquier caso creemos que ese no es

ha hecho un esfuerzo también para actuar sobre la disposición adicional primera para mejorarla en el sentido y ahí están nuestras enmiendas que no han sido asumidas y que hoy hemos reservado en este sentido dos enmiendas

para que esos procesos tengan más garantías para estas trabajadoras y trabajadores a los que

que queremos valorar su experiencia el hecho de la obligatoriedad porque tal y como está ahora mismo recogido en la ley no hay ninguna obligatoriedad

instituciones y a nosotros esto desde luego nos genera mucha desconfianza respecto a determinadas instituciones de que se vaya a hacer o no

de antigüedad etcétera además de elementos de transparencia que incluíamos que nos parece muy importante para que los propios trabajadores sepan exactamente a qué atenerse

sus puestos de trabajo y además actuábamos en otra enmienda para que la parte en la que se pretende valorar esa experiencia pudiera tener más peso en las fases de los concursos

y de méritos por lo tanto nosotros no vemos reflejado en esta parte en las disposiciones adicionales todo aquello que se podría haber reflejado para mejorar

estos objetivos dentro de la seguridad jurídica a la que ha hecho referencia la consejera y este es un elemento importante a la hora de marcar la posición hoy en la votación

de nuestro grupo respecto al contenido de la ley a su articulado lo que debería ser el objeto en realidad del debate si no hubiera este otro elemento que

pero el objeto de la ley para regular los cuerpos y escalas la verdad es que nosotros no hemos encontrado es verdad que ha habido y yo lo agradezco ha habido un talante negociador por parte

no hemos encontrado un reflejo en las enmiendas en cuanto a esa regulación de cuerpos y escalas y sobre todo

sobre algunos cuerpos y escalas que pensamos que se tenían que haber recogido y que hoy en día son muy importantes me refiero por ejemplo voy a citar

otros grupos también han propuesto otro tipo de cuerpos y escalas que nos parecían interesantes y que nosotros hemos votado a favor

de determinadas enmiendas reservadas de otros grupos porque nos parecían interesantes y que no van a estar

también habíamos propuesto que todos los puestos de trabajo fuesen adscritos a una sola escala y que la escala en vez de estar tan restringida a titulaciones

distintas titulaciones con el objetivo de que la especialidad y la capacitación se demostraran con más peso de las pruebas de acceso

específica porque algunos sindicatos también nos advertían de los problemas que el modelo que va a salir de esta ley puede generar que puede solucionar algunas cosas

nuevos problemas creemos que desde luego esta ley

los altos problemas de tasas de temporalidad pero lamentamos sobre todo que ni siquiera va a suponer un avance en ese problema por lo tanto la posición de nuestro grupo lamentablemente es bastante diferente a la de aquella con la que abordamos en un principio esta ley

pueda respaldarla y tengo que decirles que así lo lamento porque era una ley en la que desde luego

habíamos puesto empeño en que podría salir algo que desde luego

pero que fuese un avance no vemos ese avance en esta ley y por lo tanto no la consideramos en este momento

gracias presidenta buenos días señoras consejeras señor consejero

bien debatimos hoy la aprobación de la ley de los cuerpos y escalas de la administración de la comunidad autónoma de euskadi que es un proyecto que se aprobó como ha dicho la consejera

en el consejo de gobierno el uno de diciembre del año pasado y fue remitido a este

su tramitación y hoy traemos a debate un texto legal que va a cumplir sustancialmente con los objetos nucleares con los objetivos nucleares para los que se presentó

el empleo público con el objetivo de conseguir una administración pública profesional racional eficaz eficiente que responda sobre todo de la mejor manera posible

vasca pero no solamente eso porque también esta ley tiene la pretensión de facilitar como ha dicho la consejera los procesos de acceso al empleo público

a ese nuevo marco derivado de la incorporación a bolonia y por tanto de procurar una mejor ordenación de los recursos humanos de nuestra administración convendrán conmigo estoy segura señorías de que la esencia de las administraciones públicas

públicos que se prestan y en este sentido y como es obvio

trascendental no voy a entrar en los antecedentes

explicado la señora consejera en relación con la ley de función pública vasca del ochenta y nueve

ya establece y refleja esa estructura pero lo cierto es que han pasado años

y como consecuencia del tiempo transcurrido por una parte de la necesidad de adaptación de los cuerpos

de los grupos y subgrupos a esa nueva clasificación que se establece en el real decreto

de las nuevas titulaciones creadas y sobre todo también de la actualización de los perfiles profesionales de determinados puestos de trabajo se hace necesario proceder a una nueva regulación de los cuerpos y escalas y en ello estamos

está claro que es una ley absolutamente necesaria por otro lado tiene un componente digamos menos nuclear pero no menos importante y digo no menos nuclear porque en origen no estaba prevista y yo tengo una lectura distinta de este asunto que me voy a explicar

menos importante al contrario y es que pretende coadyuvar de una manera importante regular la alta temporalidad e interinidad de la que

porque efectivamente señorías el abuso de la contratación temporal en la administración es un hecho evidente

y estamos todos de acuerdo en que ha alcanzado unos niveles difícilmente asumibles nosotros desde el grupo

que es necesario absolutamente necesario creo que la ley es importante yo le doy más importancia que la que le daba el señor hernández en este caso

para dar una solución de forma definitiva y con seguridad jurídica

públicos que están sufriendo esta situación eso sí respetando los principios constitucionales de igualdad mérito capacidad y publicidad

pública la consolidación y estabilización del empleo por tanto es uno de los objetivos

perseguidos por esta norma efectivamente aunque en puridad el marco regulatorio original no preveía

y es que creo que corresponde hacer una mención a las importantes aportaciones de determinados sindicatos de determinados sindicatos podría dar el nombre pero yo creo que ellos lo sabrán que abrieron

a la consolidación a través de esta ley trasvasando las dos disposiciones transitorias diecinueve y veinte desde el proyecto de ley de empleo público

procesos especiales de consolidación mediante las disposiciones adicionales de las que viene hablando de todo el mundo

efectivamente nadie desconoce las vicisitudes derivadas de la sentencia del tribunal constitucional en relación con el apartado segundo de la disposición transitoria décima del proyecto de quinta modificación de la ley de policía que fue declarada inconstitucional y su absoluta similitud

disposición adicional segunda que preveíamos en la ley que hoy aprobamos como saben esa disposición preveía un procedimiento de consolidación en grupos de clasificación

con altos porcentajes de interinidad consistente en incorporar el proceso

un turno diferenciado de acceso para quienes cumplieran determinados requisitos obviamente a tenor

de inconstitucionalidad se consideró que era procedente

que prevé la posibilidad de realizar procesos especiales de consolidación mediante concurso en el marco

en la legislación básica y aquí de manera señorías que aquí yo desde el grupo socialista les voy a recordar que en las cortes generales

presentes en esta cámara tienen representación se está tramitando como proyecto de ley el real decreto que todos conocemos de catorce barra

de la temporalidad en el empleo público emanado del gobierno del presidente pedro sánchez que tiene un altísimo

de los y las trabajadores públicos que va a poner en pista cuestiones

si estamos hablando como todo el mundo dice de lo central que es atajar las tasas

va a poner en pista como digo un marco jurídico normativo de actualización del estatuto básico del empleado público y de otras normas para atajar la temporalidad y reducir las tasas

cómo con la eliminación de las tasas de reposición de las que tanto hablamos y con la definitiva estructuralización de las plazas estructurales

a predicar no solo a predicar a predicar con el ejemplo y también dar trigo y apoyar y crear

y finalmente pues efectivamente señalar que desde luego desde los grupos que apoyan al gobierno de una manera franca abierta directa se ha intentado

un acuerdo más global un acuerdo pero no ha sido posible a pesar de como digo de los intentos importantes serios y francos de modo que en cualquier caso toca reconocer la disposición de los grupos para el acuerdo y esta vez no ha fructificado pero en fin habrá otras ocasiones espero que en ellas consigamos

irtenbidea ematea hoy en la cav

casi la mitad de la plantilla trabajan para la administración en situación de temporalidad y en la mayoría de los casos podemos decir en situación de abuso o fraude esto quiere decir que la mayoría de estas trabajadoras y trabajadores mediante contratación temporal están cubriendo trabajos estructurales y permanentes en la administración pública

sino fruto de políticas concretas y consecuencia de un modelo de contratación que se ha aplicado durante décadas han pasado años sin que se hiciera nada mientras las tasas de temporalidad subían y se cronificaban

las escandalosas tasas de interinidad venían de antes y esto está ocurriendo en la administración general en la administración educativa

en osalan servicios públicos básicos y esenciales que se están prestando en condiciones de precariedad de inestabilidad de la plantilla y desde hace

hace ahora algo más de seis meses le interpelamos sobre esta cuestión a la señora consejera para conocer cuál eran las intenciones del gobierno porque las personas empleadas

gai hauek negoziaziorako mahai eta esparru ezberdinetan lantzen ari zela nos dijo también que la ley de cuerpos y escalas era una ley crucial para poder afrontar

a través de la convocatoria de una oferta pública de empleo en dos mil veintiuno y que precisamente por ello se había remitido con la mayor agilidad posible a la cámara de cara a su pronta aprobación nos dijo que todos los grupos parlamentarios tendríamos la oportunidad de posicionarnos con propuestas concretas y que consideraban que el proyecto tenía el aval jurídico suficiente para su adecuada tramitación

pues bien nada de esto que nos dijo la consejera hace unos meses en nuestra opinión se ha cumplido

solo una ha sido aceptada la que solicita incluir la negociación

en la elaboración de la relación de puestos de trabajo el resto ha sido rechazada se ha rechazado el cambio que hemos propuesto de denominación de cuerpo superior

a la confusión con una clasificación de titulaciones jerárquica artificial que hoy no existe

del plan bolonia como es la ya obsoleta cuerpo superior titulación superior y cuerpo técnico grado medio también se ha rechazado la enmienda donde se recoge una demanda histórica del personal de enfermería para que se les incluya en una escala de enfermería en el cuerpo superior facultativo

que hoy no existe la enfermería exige la titulación de grado que le habilita para estar incorporada como profesión también en la escala superior

en el cuerpo superior facultativa profesión integrada en un ochenta y tres por ciento por mujeres supone contribuir a ahondar en la brecha salarial de las mujeres como han denunciado representantes del sindicato en su reciente comparecencia en comisión se ha rechazado también la enmienda que recoge

para incluir este grado en la escala de economía y empresa se trataba de incorporar disciplinas afines como ya se han hecho en otras comunidades y también han sido rechazadas todas las enmiendas relativas a la regulación

extraordinarios de consolidación del empleo público temporal así como la enmienda que solicita la realización de un diagnóstico sobre la totalidad del empleo público tanto el que es necesario consolidar como el que es necesario crear

dejando sin solución la interinidad del empleo público en euskal herria bildu estamos en desacuerdo con esta disposición transaccionada por pnv pse con el pp

al presentar esta ley como el instrumento para consolidar el empleo público dando una salida a la situación como hemos dicho de más de cincuenta y cinco mil personas que trabajan en las diferentes administraciones públicas vascas y por otro lado la posición del gobierno con la transacción

elude asumir compromisos básicos para acabar con la temporalidad del empleo y se presenta ante los sindicatos y ante este colectivo de trabajadores y trabajadoras sin más oferta y sin más propuesta que no sea lo que se decida desde madrid

para poder ofrecer una salida justa a la interinidad la cual además debe cumplir como sabe con la directiva europea y las resoluciones

dos son los compromisos básicos que no se han querido incluir en la ley uno es el compromiso de tener una voluntad negociadora para acordar con las representaciones sindicales los procesos extraordinarios de consolidación de empleo en abuso o

tres son los elementos claves que deben incorporarse en este compromiso

tres años de antigüedad procesos de consolidación flexible porque como hemos dicho estos procesos de consolidación deben de servir también en los términos declarados por las resoluciones judiciales del tribunal de justicia de la unión europea para resarcir la situación de inestabilidad

durante largos periodos miles de personas empleadas públicas a la que no se nos olvide se les ha negado la opción de consolidar el empleo porque no se han convocado ofertas públicas de empleo y el otro elemento que habría que incorporar que tampoco se menciona en la ley

situar la tasa de temporalidad por debajo del ocho por ciento que es lo que nos homologa con europa

como he dicho no solo se trata de consolidar empleo sino también es necesario crear empleo por ejemplo el empleo que hoy es temporal pero como que por su mantenimiento en el tiempo y cobertura de tareas permanentes

o el empleo público necesario como consecuencia de la revisión de ratios y cargas de trabajo como ocurre en el ámbito educativo y sanitario

ninguno de estos compromisos que he mencionado quedan reflejados en esta ley y en conclusión

para euskal herria bildu la ley de cuerpos y escalas que hoy se vota es una ley fallida que nace sin dar respuesta

como es acabar con las escandalosas tasas de temporalidad en el empleo público de las administraciones vascas eta azaldutako arrazoiengatik euskal herria bilduk

que permitirá ordenar el acceso al empleo público adaptando las exigencias de titulaciones a los nuevos

y dar una mayor valoración a la experiencia de las personas que actualmente ya están trabajando en las organizaciones

todo ello en equilibrio con las nuevas incorporaciones y el relevo generacional y todo ello será clave

las próximas ope que están a la vuelta de la esquina y tanto

algunos portavoces que parece que se centra exclusivamente esta ley en una parte pues no no se puede entender una parte sin la otra

son claves no hemos podido alcanzar no hemos podido llegar hoy a un acuerdo global lo lamentamos sí que es verdad que se han aceptado ciertas cuestiones y que se ha transado un apartado importante con el grupo popular ciudadanos relativa a la disposición adicional segunda sobre procesos de consolidación

no se ha podido ir más allá en ese sentido agradecer la disposición del grupo

no vaya a apoyar la ley exclusivamente porque no se acepta una enmienda completa sobre una escala muy concreta que se refiere a la escala de instituciones penitenciarias cuando usted señor gordillo dice que esta ley

no la van a apoyar exclusivamente por no aceptar una escala de instituciones fíjate de todo lo que habla esta ley de toda la ordenación de cuerpos y escalas de todo el sistema que va a evitar un montón de recursos

se acepta una esa escala concreta que además se hizo un ofrecimiento parcial que ustedes no la rechazaron porque querían quedarse en la integridad pero bueno no lo compartimos pero entendemos que es su estrategia política y en cuanto al resto de grupos pues bueno agradecer la disposición realmente y sinceramente

tanto elkarrekin podemos se ha mantenido en su postura inicial y no ha habido forma aunque se ha ofrecido modular ciertas cuestiones

que se atiende a otra estrategia en cualquier caso el recorrido de esta ley y su contenido actual no es casual ha evolucionado no de forma caprichosa sino para adaptarse

garantía jurídica una tramitación completa que empezó en el gobierno vasco con el equipo anterior y que ha continuado con el equipo actual que tuvo un acuerdo o un apoyo mayoritario de la representación sindical en el que se incluyeron esas dos disposiciones sobre consolidación que inicialmente se contenían en la ley de empleo público

en el gobierno vasco con todos sus documentos con negociación sindical y eso no quiere decir que los instrumentos de desarrollo a partir de mañana no se siga negociando

y además con un acuerdo el consejo de gobierno aprobó a finales del año dos mil veinte el proyecto de ley

que el gobierno vasco ha sido pionero en esta materia a pesar de las limitaciones externas sobrevenidas y en esa tramitación parlamentaria

sucesivas prórrogas de enmiendas ponencia comisiones y hoy llegamos al pleno llegamos al pleno con una ley condicionada en su contenido eso no lo podemos discutir pero por el nuevo contexto jurisprudencial y normativo pero no por ello sin utilidad no por ello una ley fallida como

con una gran utilidad y en este recorrido en este contexto en este

sustancial o determinante la sentencia del tribunal constitucional como decía la consejera

de euskadi aprobada por este parlamento en el dos mil diecinueve y esa sentencia anula una disposición idéntica o muy parecida a la que contenía

estima que este parlamento no tiene competencia hasta que se modifique la legislación básica del estado nosotros nos manifestamos en contra de aquel recurso constitucional igual que lo hicieron los servicios jurídicos de la cámara en defensa de la ley aprobada por el parlamento y el propio gobierno vasco

consejera presentaba el proyecto de ley en el parlamento se conoció unos días más tarde dicha sentencia que anulaba precisamente un contenido que contenía ese proyecto de ley

falta de voluntad política es una realidad el contexto ha cambiado y aquí no podemos

contra la pared estamos hablando de cuestiones muy serias no queremos ni podemos hacer perder

a tantas personas que se están jugando su futuro o que están que tienen

en el aire aquí estamos buscando opciones opciones serias con garantías jurídicas y así eaj pnv en sus diferentes ámbitos sigue dando pasos

el estado y ahí se está modificando la legislación básica por un lado con una revisión del estatuto básico del empleado público del ebep como conocemos y por otro lado con los presupuestos generales del estado que también incluyen alguna previsión de legislación básica en materia de empleo público que en los últimos años parece que está siendo tendencia en esa llamada

otra cuestión en cualquier caso el grupo nuestro grupo en el congreso participa y negocia en ambas líneas tanto en la reforma del ebep como en los presupuestos generales del estado principalmente en dos líneas en la de concretar

esos procesos de consolidación pero hablando de personas y de consolidar a personas no de consolidar puestos en cualquier caso seguimos avanzando y por otro lado en la de eliminar las tasas de reposición o conceptos análogos con otros nombres

capacidad de autoorganización y bueno pues esperamos que fructifiquen

para reducir la temporalidad y en concreto a la administración a las administraciones públicas de euskadi

falta de voluntad en euskadi no es que hay una realidad que es que una sentencia hace dos días ha dicho que hay que modificar esa legislación básica del estado

es la que es y el segundo ámbito en el que estamos es en euskadi que seguimos avanzando que no podemos paralizarnos que hay aspectos en los que sí podemos seguir

regular como es esta ley porque tenemos unas ope a la vuelta de la esquina que no se pueden paralizar y el señor hernández decía que no va a haber mucha diferencia de tiempo entre

esta ley tiene que regular aspectos que tienen que contener las ope que tienen que

normativa que en este momento tenemos en vigor con lo cual los tiempos son sustanciales y no podemos paralizarlo y en eso estamos en eso de eso va esta ley y

la importancia de esta ley por un lado en el ámbito de en el objetivo de cuerpos y escalas de ordenación

de cara a formación y titulaciones que va a evitar muchos recursos que va a evitar perder mucho tiempo a la gente por otro lado el tema del asunto de la consolidación a través de esas dos disposiciones adicionales la primera que da mayor valoración a la experiencia sobre todo

convocante y por otro lado la segunda que da una posibilidad para que las administraciones públicas vascas convoquen procesos de consolidación

se entiende que en este momento no se puede y además parte corresponderá también a la negociación sindical

y todo ello siempre dentro del marco que resulte de la normativa

presentada por el grupo socialista y nosotros euzko abertzaleak que es relativa a la jubilación del personal que establece criterios comunes para todas las administraciones públicas de cara a la jubilación ordinaria o la prórroga en el servicio activo

es una ley con unos aspectos concretos y efectivamente el modelo completo del empleo público vasco se contendrá en la ley de empleo público de euskadi que se está tramitando en este momento en el parlamento eta horregatik guztiagatik

eskerrik asko tomo la palabra para hacer referencia a tres elementos en relación a lo comentado por la señora larrauri en su última intervención en primer lugar sobre las referencias al acuerdo sindical que yo también he hablado de él por el que estaban incluidas en esta ley estas disposiciones adicionales un acuerdo

aceptaban que estuviera en esta ley por qué una ley en la que algunos sindicatos decían no estamos de acuerdo con la ley pero si se recogen estas dos disposiciones adicionales de mínimos

así lo han explicado por qué consideramos que está caduco y además así lo hemos entendido cuando han vuelto a pasar por esta comisión en esta legislatura primero evidentemente porque la disposición adicional segunda

no voy a entrar en el debate de la responsabilidad que tiene que tener cada grupo o el gobierno respecto a una disposición que podemos saber que va a ser declarada inconstitucional pero eso es un elemento que demuestra que también está caduco

ese acuerdo sindical porque además esa disposición era la más importante

para los sindicatos independientemente de en quién pongamos la responsabilidad de por qué no está en la ley

la consejera creo que sí y en segundo lugar porque algunas de las mejoras que también los agentes sociales nos proponía respecto a la disposición adicional primera por ejemplo

pero también respecto a la disposición adicional primera diferentes grupos hemos actuado a través de nuestras enmiendas aquí nuestro grupo ha sido

muy pragmático nosotros no hemos hecho enmienda a la disposición adicional segunda teníamos las propuestas de los sindicatos para modificarla hemos hecho a la primera dentro de esos límites jurídicos a los que la consejera ha hecho referencia la señora

también con elementos que podrían concretar mejor esos procesos

obligatoriedad y otro el de los tres años de referencia de antigüedad la señora larrauri yo no sé si

y lo ha dicho no se puede porque corresponde a la negociación colectiva se puede o no se puede se puede

corresponde a la negociación colectiva o si sería mejor pero es que estos elementos que incluimos

sobre la mesa o lo han puesto sobre la mesa diferentes agentes sociales que lógicamente lo van a llevar a la negociación colectiva una negociación colectiva que también le han pedido al gobierno

y de antes de la aprobación de la ley porque efectivamente y en eso coincido con la señora larrauri para algunos procesos queda muy poco tiempo el año está a punto de acabar y además creo que ya sabe perfectamente

esta actitud pragmática precisamente por eso porque sabemos que detrás hay muchas trabajadoras y trabajadores que dependen de ello de estos temporales

no tenemos ninguna garantía de que esto vaya a ser se vaya a traducir en procesos de consolidación

en esas instituciones de aquí a final de año va a depender de voluntad política

pues en la oposición nos parece que esto recogido en la ley como nosotros proponíamos daba más garantías simplemente voy a hacer referencia a algunas de las enmiendas que hemos reservado y que pedimos el voto a favor y que no he mencionado antes la de escala de igualdad de género sí y la de escala de trabajo

que no la he mencionado antes y que nos parece importante que estuvieran

nueva regulación y luego una cosa que para mí tiene una cierta importancia creo que lo sabe también la señora larrauri porque lo hemos hablado lo saben todos los grupos porque lo hemos hablado

porque esto en la administración pública pasa como en la empresa privada los auxiliares administrativos todos sabemos

hacen tareas de administrativos con condiciones y salarios peores y creemos que una ley como esta también tiene que buscar pues eliminar

y pensamos que esta medida iba encaminada a eso y son lógicamente las categorías que menos salarios tienen

dentro de una ley que atienda cosas seguramente mucho más importantes besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

kalitatezko zerbitzu publikoak garatzeko helburuarekin la falta de respuesta a la interinidad desde el ámbito político ha llevado a muchas personas empleadas públicas

de la seguridad jurídica los partidos del gobierno justifican que esta ley no ofrezca solución alguna a la temporalidad son muchas las resoluciones judiciales

por infringir la normativa interna y la directiva europea en materia de contratación temporal

generar falsas expectativas pero eso debiera de servir también para que este gobierno se abstenga de hacer propaganda con ofertas públicas de empleo que no se llevan a cabo nunca la irrupción del tribunal constitucional mediante su sentencia cuestionando la capacidad competencial

basados en empleo de calidad y dimensionados en atención a nuestra realidad y necesidades de la sociedad vasca exigiendo para ello al gobierno español que respete nuestro ámbito de decisión todo ello tal y como se expresaba en la enmienda transaccionada entre euskal herria bildu y podemos el veintidós de abril pero que tampoco recibió la aceptación de los partidos del gobierno

tampoco ha ayudado la falta de voluntad política de los partidos del gobierno

el gobierno no ha demostrado hasta la fecha ningún talante negociador con los sindicatos y ha mantenido una posición cerrada y ahí está una huelga en los servicios públicos vascos el veintidós de abril convocada por todos los sindicatos el acuerdo sobre nuestras enmiendas

los elementos que comprometen para dar una solución justa a las trabajadoras y trabajadores internos no ha querido y estos elementos vuelvo a repetir son dirigir estos procesos de consolidación a personas en temporalidad con más de tres años de antigüedad procesos de consolidación flexible

mantenerse en el empleo y vuelvo a insistir fijar el objetivo de poner por debajo del ocho por ciento la tasa de temporalidad en las administraciones públicas vascas que es lo que nos homologa con europa y estos elementos no se han querido incorporar en la ley

pero estos elementos no se los ha inventado euskal herria bildu son los que se derivan del cumplimiento de la directiva europea sobre la prevención del fraude en la contratación temporal

interno y las garantías jurídicas también derivan del cumplimiento de las mismas

la realización en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor un diagnóstico no solo del empleo público temporal como he dicho antes

todo ello mediante la negociación con las organizaciones sindicales esan bezala ez da borondate politikorik egon enplegu publikoaren behin behinekotasunari gaiari

bueno sin más una pequeña referencia señor hernández que usted ha participado en el segundo turno

es verdad que ya se trasladó el motivo de la no aceptación de las enmiendas tanto en las reuniones que tuvimos como luego en ponencia y comisión pero en relación a la de igualdad por ejemplo la de creación de la escala de igualdad que usted ha nombrado

eso se podía modular pero desde luego lo que se decía es que

el tema de la especificidad de la igualdad se abordará en momentos posteriores

y no es necesario la creación de una escala evidentemente hay una titulación hay una especificidad

especificidad en momentos posteriores y luego el tema de la consolidación que usted dice es que ustedes concretan querían concretar demasiado en este momento y nosotros lo que decíamos y de hecho se ofreció el poder llegar a un acuerdo entre su primera y nuestra segunda

tanto esos aspectos que están dependiendo en este momento de la legislación básica del estado y por otro lado es que nos es contradictorio que por un lado se dependa y que no se pueda aquí legislar con rango de ley ciertas cosas que están pendientes de la legislación básica del estado con que además

es que por un lado depende y por otro lado será materia de la negociación colectiva y en cuanto a su posicionamiento en la ley ustedes se han puesto de perfil ha sido mucho más cómodo

que otros solucionen y que otros den solución a los problemas en este caso del empleo público y para reducción de la temporalidad y eso va por todos los grupos mucho más fácil que otros aprueben y nosotros mantenernos en la crítica

o en el no eterno manteniendo unas posiciones maximalistas

ley con oposición sindical eso no es cierto no es cierto no no lo es esta ley tuvo el pase en su momento de la mayoría sindical lo tuvo y además es que le corrigió una representante sindical hace un par de semanas

sindical con lo cual había tenido el apoyo mayoritario de la representación sindical si así es otra cosa es que ahora por el contexto que todos conocemos y desde luego no ni por este grupo parlamentario ni por el gobierno vasco el contexto haya cambiado y el contenido haya quedado limitado por esa sentencia que décimos del tribunal constitucional que no es un capricho

voluntad política y eso tampoco es cierto no hay voluntad política no es una realidad es una realidad que los marcos competenciales son los que son y ustedes ya deberían actualizar

claro nosotros estamos en defender nuestras competencias y en potenciar el autogobierno pero deberían ya actualizar ese discurso de es que estamos sumisos al estado ustedes son los que día tras día se están haciendo fotos los primeros yo yo voluntario yo el primero para hacerse fotos con el gobierno del estado

en materia de empleo público sin ver una condición y tampoco sabemos

alguna cuestión para reducir la temporalidad en euskadi con lo cual

no digan no hablen de la falta de voluntad de otros desde luego nosotros apostamos por seguir dando soluciones buscando soluciones para reducir el empleo público

en euskadi y ahí les tendemos la mano tendemos la mano a todos los grupos para seguir buscando soluciones

nosotros no podemos hacer otra cosa que defender esta ley y en este caso agradecemos la voluntad o el trabajo realizado por el gobierno vasco en su departamento gobernanza en el equipo anterior equipo actual los compañeros y compañeras

de la cámara apoyo técnico jurídico que han permitido que esta ley llegue hoy

al pleno y porque entre todos hemos conseguido efectivamente que esta ley llegue hoy al pleno y en lo que a mí respecta

aquí a defender este punto por mí avanzado estado del embarazo lo cual sí ha sido posible y me satisface mucho

buenos días señorías lo que décimos desde vox es que bienvenida sea euneiz bienvenidas sean las empresas y entidades que están detrás

desde vox ya lo dijimos en la presentación del proyecto de ley de reconocimiento de euneiz como universidad privada y hoy volvemos a insistir en ello la educación es un pilar fundamental sobre el que se desarrolla el futuro y la prosperidad de nuestra nación

a la hora de elegir sus estudios en las universidades que consideren

o sean privadas como sociedad lo importante es conseguir que las nuevas generaciones estén bien formadas que aspiren a alcanzar sus metas de la mano de los mejores especialistas de los mejor formados y de los más experimentados aspirar a la excelencia es lo que hace grandes a profesionales sea cual sea su ámbito de competencia

rechazamos las objeciones que estén basadas en criterios políticos y partidistas así como el debate sobre lo público y lo privado porque lo importante

imparta calidad y también imparta aparte de calidad excelencia por lo cual aprobaremos este proyecto gracias eskerrik asko martínez

gracias presidenta lehendakari consejeros señorías buenos días a todos y a todas señora presidenta hoy es un día importante yo creo que es un día histórico también la aprobación de una ley lo suele ser un día histórico es aprobar una ley pero esta tiene unas características especiales

la universidad privada se convierte en una nueva universidad para enriquecer nuestra vida educativa y nuestra vida cultural

conocimiento y para hacer una propuesta desde la iniciativa privada orientada a la formación orientada a la capacitación profesional especializada además en nuevos ámbitos

y es un día histórico para el país vasco y para esta ciudad para vitoria esta ciudad se engrandece aún más con esta nueva aportación universitaria es un éxito social como lo es la implantación de una gran empresa como es la implantación de un gran centro logístico

es decir es un éxito social esta nueva realidad universitaria y siendo además de iniciativa privada es una expresión de que

y quiere aportar ideas propuestas nuevas que la desarrollen el consejero aquí presente tiene que sentir también hoy una gran emoción ha acertado con el impulso de esta universidad euneiz y hoy

con la aprobación de su ley de creación esta ley va a establecer perfectamente el marco de actuación

su actividad junto con el resto de la normativa que afecta al sistema universitario en el que esta nueva universidad se integrará tenemos que agradecer

y el hecho de enriquecer nuestra proyección académica y educativa un compromiso que se traduce en importantes inversiones en creación de empleo en atracción de estudiantes de otras partes y

el mapa universitario vasco en el que ha de convivir esta nueva universidad con la universidad del país vasco con la universidad de deusto con la universidad de mondragón

con esta nueva expresión privada estamos efectivamente ante una fuente de oportunidades y de actividad creativa e innovadora eso está así es una oportunidad que desde luego

mi grupo no presentó enmiendas al entender perfectamente válido el acuerdo que había alcanzado el grupo promotor los promotores de euneiz con el gobierno vasco en torno al proyecto de ley

eso sí las enmiendas del grupo nacionalista vasco el grupo socialista por ser también parte del acuerdo con los promotores y por las nuevas expresiones normativas

era lógico y por eso mismo votamos a favor de esas enmiendas como haremos ahora en el conjunto del dictamen lógicamente en ese sentido votaremos en contra de las enmiendas como ya lo hicimos en comisión de las enmiendas que mantiene

en relación con el ánimo de lucro también lo hicimos en contra de la enmienda a la totalidad que presentó elkarrekin podemos porque vamos a ver el haber gestionado bien

esta experiencia universitaria en otras partes de españa el haber gestionado bien esta experiencia

en concreto en cataluña les ha llevado a poder invertir en vitoria a poder invertir en el país vasco

otras universidades privadas también invierten en otras partes del mundo

de universidades que aquí conocemos cómo se invierte en otros sitios por nuevas fuentes de conocimiento es decir si se han obtenido beneficios

estos se han invertido en crear aquí una universidad es decir se han empleado en seguir haciendo universidad y hemos sido nosotros los beneficiarios en ese sentido

universidad sea de calidad respete las normas que es lo que es su compromiso y ese es el elemento fundamental desde luego está claro que estas enmiendas

como la enmienda de totalidad que presentó se mueven en esa desconfianza patológica por iniciativa privada desde luego algo que desde el grupo popular ciudadanos no compartimos nosotros sabemos y vemos que este tipo de iniciativas son expresión de una sociedad viva de una sociedad potente de una sociedad que se enriquece

al conjunto o sea que por eso votaremos a favor es una gran noticia para vitoria y para el país vasco

desde elkarrekin podemos izquierda unida desde el primer día fuimos críticos con el proyecto pero no por una patología contra la universidad privada ni contra el sistema de enseñanza privada fuimos críticos porque los argumentos que

los sindicatos de la enseñanza universitaria como el alumnado de la enseñanza universitaria en euskadi como la de expertos y expertas que han venido a comparecer en la ponencia han señalado claramente

ez duela betetzen araudia no cumple los requisitos mínimos para ser una universidad no cumplía los anteriores requisitos que estaban establecidos en el real decreto anterior del gobierno del estado y mucho menos cumple

no cumple ese real decreto eso el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi especialmente

cumplen y se va a aprobar y las enmiendas redactadas por la empresa y presentadas por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi que por cierto llegaron antes a algunos grupos que al resto también hay que decirlo

resuelven los problemas que tiene este proyecto de ley porque el hecho de quitar las menciones a las facultades y a los grados que va a tener esa universidad no oculta

presentada al gobierno vasco que según unibasq y según datos objetivos comparativos con el real decreto en vigor no cumple para ser acreditada como universidad ustedes lo saben se va a aprobar no pasa nada esperemos que todo vaya muy bien pero

esos uno de los elementos que hemos hecho referencia durante todo este tiempo es que no cumple los requisitos mínimos para ser

nunca como una universidad siempre hemos dicho que no nos íbamos a negar a que

en ningún caso como una universidad como tal porque no cumple los requisitos

y que están también cerca de cumplir los requisitos del nuevo real por la experiencia y por otro tipo de circunstancias pero este centro universitario en ningún caso eta zergatik ere izan gara kritikoak sistema edo proiektu

de esa libertad para poder pagar ocho mil euros un curso frente

dependerá de la caridad como se ha referido el propio promotor que va a haber algún sistema de becas o sea que ahora

de la buena voluntad de los promotores de ese centro universitario

la verdad que no nos parece gaurko egun honetan

puntu pero sobre todo y también lo volvemos a decir porque se introduce el ánimo de lucro en la enseñanza superior vasca y por último porque además este proyecto por mucho que se nos diga por mucho que se quiera engañar a la gente que es lo que está intentando hacer

este proyecto aspira a recibir fondos públicos por dos razones la primera porque va a entrar en el sistema universitario vasco y por tanto

puede pedir dinero público al gobierno vasco para financiar sus

peligro bastante grande para nuestro país porque vamos a tener que financiar una universidad privada con ánimo de lucro no es lo mismo en las otras universidades de iniciativa social que tenemos en euskadi y segundo por ese proyecto

que podrán engañar a alguien a mí no y estoy seguro que a la mayoría de la alavesa tampoco un proyecto que aspira a recibir más de treinta y dos millónes de euros de dinero público a través de los fondos europeos y si no seguramente se presente

que tiene el mismo promotor el mismo que se dedica a la enseñanza superior

en salud en terapias de fisioterapia y en nuevas tecnologías y en videojuegos

presentada y nos dicen que son dos proyectos diferentes y además se van a desarrollar en el mismo sitio geográfico yo si pretenden engañar a alguien está muy bien conmigo no lo han conseguido con mi grupo tampoco y estoy seguro

siga adelante tampoco y además voy a negar la mayor este proyecto no va a beneficiar al conjunto de la

y segundo es un proyecto destinado a que alumnos extranjeros vengan a araba no a que la ciudadanía alavesa se forme en la universidad que

accesibles por tanto por todas estas razones berriro diogu

jasotzeko euneizek izango du aukera hori pero lo curioso lo curioso es que euneiz al parecer

dinero público no va a pedir al parecer insisto ayudas económicas públicas a preguntas realizadas en comisión a los promotores de euneiz

si iban o no a solicitar algún tipo de ayuda tanto a gobierno vasco a diputación de araba o a ayuntamiento de gasteiz y la respuesta de los promotores

desde el punto de vista económico volvemos a reiterar dijeron no hemos planteado ni vamos a plantear como proyecto el recibir subvenciones o ayudas públicas para el desarrollo de nuestro proyecto horrekin gelditzen gara gu no sé si será casualidad o no pero hoy es hoy se juega el extra de la once el cuponazo y algunos sin jugar ni un solo cupón les ha tocado la lotería pena bat

al inicio de este trámite administrativo en noviembre de dos mil dieciocho existía una normativa en vigor en torno al reconocimiento y creación de universidades en el marco estatal normativa que fue modificada

e iniciada también la tramitación parlamentaria o legislativa del mismo en marzo ante esta

la posibilidad a través del trámite de enmiendas de junto al grupo socialista

y emanase del órgano que emanase y es que como hemos comentado también en más de una ocasión será a posteriori una vez aprobada la ley en esta

que le sea también de aplicación y de todo ello será garante junto a otros organismos y entidades el departamento de educación del gobierno vasco como lo ha sido a lo largo de todo el trámite también

jartzen dugu porque estamos hablando de un proyecto positivo para euskadi atractivo enriquecedor generador de talento y también de oportunidades es decir un proyecto tractor

arloetan contaremos por tanto con otro referente más en euskadi a nivel de formación talento internacionalización

todas ellas son fundamentales también para construir la sociedad a la que aspiramos en euskadi una sociedad avanzada y moderna

de vitoria gasteiz un lugar de referencia para continuar desarrollando y formando a cada vez más personas y profesionales

y mejorar nuestra capacidad competitiva reconocemos y damos la bienvenida por tanto a esta nueva universidad a euskadi ongietorriak betiere azpimarratuz

es un complemento creemos a la universidad pública que también aportará

en la innovación educativa el conocimiento la investigación por lo tanto creemos que son complementarias y que además tienen un objetivo común que no es otro que el de formar de la mejor manera posible

se han dicho algunas cosas que yo creo que mire señor arrese

de inversión privada en una experiencia universitaria y eso sí que ha sido una suerte que nosotros seamos los beneficiarios

invertido en infraestructuras universitarias en organización en empleos en puestos de trabajo en atracción universitaria es decir eso

bien empresarial ligado a lo universitario pero eso es bueno y eso va a ser beneficioso así que

suerte además es que se ponen sobre la mesa muchos argumentos que parece que son verdad y no lo son es decir es que cumple los requisitos lo cumple lo han dicho las agencias calificadoras

o sea cumple los requisitos y además es un compromiso el hecho de tener que ir trabajando todos tenemos que seguir cumpliendo las leyes todos si hacemos una sociedad del carácter que sea tendremos que cumplir las leyes es decir habrá unos requisitos

para comenzar a trabajar y actuar y además les vale todos los argumentos que si aventuran ya el precio de la matrícula no sé es decir aquí hay precios

ha dicho el basque culinary center tiene nueve mil quinientos euros de matrícula lo acabo de mirar ahora mismo o sea que quiero decir que

de becas a la que se han comprometido también los promotores o sea que eso lo iremos viendo también lo iremos analizando y viendo si es definitivamente exitoso o no

que puedan formar parte de la iniciativa de esos promotores pero si son proyectos beneficiosos

que va a ser también enriquecedor que va a suponer inversiones en materia deportiva

una universidad especializada en deportes con otro proyecto

como que son proyectos que están llamados y que tienen vocación de colaborar y de enriquecer la vida deportiva en este caso del país vasco o sea que en ese sentido yo creo que

que se mejore determinadas disciplinas en álava que se profundice que se invierta

los estudiantes quienes decidan si van o no a esa universidad si les interesa o no

esperemos que vayan muchos y que les interese ese es el elemento fundamental

el desarrollo de otras universidades en relación con el desarrollo de la universidad del país vasco esto no es una amenaza esto es una oportunidad esto es un reto para

qué nichos de conocimientos se pueden abordar ve que la iniciativa privada los aborda

es decir han dado ustedes un rosario de incumplimientos y aún no se ha puesto en marcha eso no puede ser no es justo entendemos que lo que tenemos entre manos es una buena noticia y vamos a darle esa oportunidad nosotros desde luego se la damos esa oportunidad serán las instituciones también las que velen por el cumplimiento de la normativa muchas gracias

señor barrio para acceder a una universidad no parte

euros creo que estará de acuerdo según la ocde en españa tardaría

en ascender a una situación mejor o de clase media si podemos hablar en esos términos eso es lo que además

son las distintas redes educativas sobre todo también en la enseñanza obligatoria y también en la enseñanza

porque acceder a un nivel de enseñanza superior privado muchísimo más caro y con muchísimos más recursos genera a través de la propia red de contactos que haces en la universidad tengas mejores posibilidades de colocación en determinados lugares y se reproduce esa escala social de ricos para ricos que siguen siendo ricos y pobres que siguen siendo pobres

poder leérmelo entero que también analiza lo que pasa

pues lógicamente nosotros no compartimos el modelo del basque culinary center que

lógicamente no lo compartimos eso no es accesible para el conjunto de la ciudadanía no es lo mismo

por cierto muy buena o alguien que pueda ir al basque culinary center no es lo mismo por tanto no es igual

porque la renta determina la posibilidad que tienes de elegir la universidad superior que quieres que puedes acceder por tanto por eso estamos en contra de este proyecto esa es la primera razón ideológica y económica y de clase

legales establecidos por el ministerio de universidades y establecidos por ley por ese real decreto

no cumple quitarlo de la ley no hace que la memoria a la universidad

el plato lo vamos a pagar entre todos y entre todas a ver quién se hace cargo de esas instalaciones si este proyecto

creo que justo este proyecto va en contra de todo lo que usted generalmente trabaja en materia del deporte de base porque no va a trabajar con el deporte de base de araba esta universidad

va a trabajar con talento internacional y excelencia internacional quien se lo pueda pagar

en gasteiz quién va a pagar esa matrícula o quién va a pagar lo que cuesta la estancia privada que está prevista en ese proyecto pues estoy seguro

la formación por ejemplo en materia deportiva a lo que usted se refería

en araba de deportes por qué no lo podemos hacer así por qué no esos treinta y dos millónes de euros que el gobierno vasco está pidiendo a europa no se hace

de araba y se pone en manos de las decisiones de un privado

importante en ese sentido y esto no va a beneficiar al deporte de base de araba beneficiará igual pues a uno o dos la excepción pero no al conjunto del deporte

la excelencia y la profesionalización sino que tiene otro tipo de valores para desarrollar en el mundo del deporte por tanto sé que no voy a convencer a nadie pero creo gaurko eguna berri txar bat

es el dinamismo empresarial llevado al sistema universitario llevado a la universidad

vamos a votar en contra de esta universidad alderdi jeltzaleko ordezkariari dagokionean harritu nau

determinamos que no era procedente aprovechar este proyecto de ley para modificar la ley tres barra dos mil cuatro del sistema universitario vasco porque ese es otro debate más profundo y dijo usted no creemos que deban utilizarse las disposiciones adicionales a través de enmiendas

es de forma y no de fondo vayamos al fondo a ver si queremos que el sistema universitario vasco tenga universidades con ánimo de lucro o no es más en este sentido aprovecho para decir que mi grupo euskal herria bildu hoy mismo

va a registrar una proposición de ley para cambiar el sistema universitario vasco para cambiar para modificar la ley tres barra dos mil cuatro del sistema universitario vasco blindarlo y dejar fuera a las universidades con ánimo de lucro por lo tanto el debate llegará

sobre el ánimo de lucro el debate llegará y tendremos que responder a una simple pregunta queremos quieren ustedes partidos que sustentan el gobierno que en el sistema universitario vasco haya universidades con ánimo de lucro sí o no traeremos una ley

y debatiremos sobre esta cuestión para euskal herria bildu hoy sí hoy

de ser a nivel universitario un territorio libre de ánimo de lucro en cuanto a la universidad

y hoy no pierde euskal herria bildu hoy por desgracia pierde nuestro sistema nuestro ecosistema universitario dena den jarraituko dugu euskal herriko unibertsitatea

niego la mayor edo que no cumplen los requisitos esta nueva universidad

quién para decir qué o determinar que esta universidad cumple o no cumple con la normativa porque desde luego no creo que quede claro tampoco ni siquiera

que fue iniciado en dos mil dieciocho con una normativa y un marco reglamentario en vigor y que

han cambiado con el propio trámite administrativo iniciado incluso el trámite parlamentario como he dicho en mi intervención y desde luego creo

para poder adaptar las nuevas universidades a las exigencias de este nuevo real decreto por lo tanto desde luego por parte de nuestro grupo deseamos obviamente no podemos hacer otra cosa que esta universidad cumpla con

lo ha deseado en su intervención porque será una buena noticia para todas

de la toma en consideración de la aprobación de este proyecto de ley por dos motivos porque a nosotros nos gusta cumplir la ley aunque no nos satisfaga totalmente y entendemos que este proyecto de ley que hoy hemos aprobado lo cumple de forma satisfactoria es verdad que ha habido dudas que ha habido polémica sobre si cumplía el cien por ciento de los requisitos o no y es verdad además que la situación legal ha cambiado a partir

que endurece los criterios necesarios para dar el visto bueno a

algo que por cierto no es algo que no exista en el resto de españa existen multitud de universidades privadas y a mí me resulta un tanto gracioso

ánimo de lucro dígame usted qué iniciativa privada de este país sale con ánimo de bancarrota ninguna ninguna por lo tanto eso es un discurso

yo creo que hay posibilidades y además el dictamen nos parece que mejora la situación que se daba anteriormente porque recoge la posibilidad de que una vez que el órgano competente que es este parlamento la cámara legislativa vasca

tiene un periodo de tiempo para acomodar su situación sus estatutos sus requisitos legales a la nueva realidad jurídica que existe en euskadi y ahora mismo

por parte del ministerio de universidades por lo tanto creo que dramatizar demasiado este asunto

y huye de la realidad pues se puede encontrar con serios problemas

no parece que sea precisamente una universidad que mantenga tasas asequibles o de carácter social y nadie duda del beneficio que aporta

en el ámbito gastronómico que tiene que tener los elementos suficientes de salvaguarda para que cumpla los requisitos establecidos por la ley por supuesto

o quien fuera lo hará en cualquier manera y no entiendo por parte de bildu que se trate de demonizar el que exista una universidad privada en el ámbito universitario vasco en el ámbito educativo a mí no me gustaría que fuese así pero lo es existe

que son de carácter privado y que funcionan con conciertos con la administración educativa eso no está mal parece ser pero sí está mal que una universidad

a entrar dentro del sistema educativo por lo tanto un poquito de coherencia

y olvidar otras realidades de las que se trata de eludir

por lo tanto un poquito de seriedad un poquito de sentido de la realidad y de sentido común

hacer meros discursos de propaganda para no se sabe qué parroquia muchas gracias eskerrik asko pastor jauna gai zerrendako

alternativas para una vida mejor y más digna y toca hacerlo como país diría que en estos momentos tenemos grandes retos que todas y todos identificamos

que todos ellos pasan por garantizar políticas públicas para el buen vivir y la justicia social

principales misiones porque como dijo amaia orozko en este parlamento

bideak sustatuko genituzke y la diferencia es

el salario minimo debe ser el sesenta por ciento del salario medio y en nuestro caso serían mil doscientos sesenta y tres aproximadamente

sería un nuevo impulso para los derechos sociales y laborales eta horregatik asmoak eta asmo horiek norabidean aritzeko konpromisoak

presidenta señorías siempre es de interés en el parlamento vasco hablar de europa hablar de la unión europea y hablar de lo que significa ese espacio para la política

para las políticas públicas para las políticas económicas sociedades etcétera efectivamente la carta social europea

de este asunto y tiene un elemento adicional de importancia que ya se venía haciendo

al derecho internacional esos principios y derechos que se establecen en la carta social europea que son hasta treinta y uno y que abordan

infinidad de materias tanto en el derecho al trabajo y a las condiciones de trabajo como en el derecho a la salud a la protección de la infancia a las pensiones

en fin a todos aquellos aspectos de carácter económico y social que entran dentro de lo que hemos llamado ese modelo de bienestar y dentro de lo que hemos denominado esa calidad de vida digna para las personas la carta social europea no solamente es el tratado internacional más importante que hay

internacional más importante que hay en el mundo por la cantidad de países a los que acoge por el compromiso colectivo que se establece y porque de alguna forma es

lanzado al mundo no solamente a la unión europea para decir que la vida en el planeta tiene que ser con reglas tiene que ser con derechos tiene que ser con principios

que ese conjunto de reglas de derechos y de principios se pudieran observar colectivamente viejo continente y en los demás continentes ciertamente a la carta social europea ya estamos adheridos ya estamos unidos

está ratificada por el estado es una carta que afecta al conjunto de los estados de la unión europea el estado español ya ha hecho esa ratificación y por lo tanto a partir de ahí este parlamento vasco

de las instituciones de toda españa están afectadas están adheridas

a esa carta social una carta social en la que cogidos los treinta y uno principios y derechos se puede afirmar con rotundidad que sobre todos ellos se trabaja desde las políticas públicas que a todos ellos se atiende desde las políticas públicas más allá de las divergencias o diferencias naturales

de la vida económica y la vida social y más allá de donde quiera colocar uno los planteamientos concretos o las reivindicaciones concretas de cada uno

pero en todos ellos se está trabajando no hay ni un solo de los treinta y uno principios y derechos

sobre los que tanto el gobierno de españa como el gobierno vasco el parlamento

no venga trabajando valdría citar todo el planteamiento de carácter político económico y social que se ha volcado en relación a la protección

valdría citar esta nueva política de la unión europea disponiendo recursos

económica justa que dota a los países y entre ellos a los que más lo necesitan de recursos adicionales para modernizar su modelo económico y también para asegurar y garantizar su modelo de protección social por lo tanto en fin hay cantidad de iniciativas y de elementos

que en realidad se viene trabajando desde el inicio de la democracia que hay un conjunto de disposiciones y de leyes que se han ido adoptando para que esto fuera así y bastaría hablar de la subida del salario mínimo interprofesional que ha tenido una subida importantísima en los últimos años

antes de que termine esta legislatura bastaría hablar del ingreso mínimo vital

un interés por dotar a las personas con menos recursos de medios para poder vivir bastaría hablar de la reforma o de la revalorización de las pensiones hecha recientemente mediante el diálogo social

ese poder adquisitivo y por asegurar esas pensiones a futuro

o bastaría hablar de la ley de vivienda y el derecho subjetivo es decir tenemos infinidad de elementos concretos

sectorial que están incidiendo constantemente y además tratando de impulsar constantemente esos derechos y principios hacia el futuro intentando cada uno en función también de su propio

ideológico y programático de lo que tienen que ser todas estas cosas intentando ampliar mejorar hacia como decía por lo tanto ya estamos trabajando en la carta social de derechos europeos lo estamos haciendo desde hace varias décadas lo seguiremos haciendo los presupuestos de la comunidad autónoma vasca son también en este año una expresión de impulso en relación a esos objetivos y por supuesto que nos sentimos totalmente comprometidos con ella porque en la práctica es lo que venimos haciendo y además

a la carta social europea la forma de unirse a la carta social europea también es respetando el espacio político en el que cada uno está que es evidente que para que la carta social progrese hay que respetar este planteamiento en el que

que efectivamente nace de una constitución ese nivel competencial que tienen las comunidades autónomas en este caso el autogobierno de la comunidad autónoma vasca a través del estatuto

u otras competencias que están en función de cómo se

una sociedad porque incluso hay muchas materias que corresponden al diálogo social al entendimiento entre los sindicatos de los trabajadores y las organizaciones empresariales a la ratificación posterior por parte de los gobiernos correspondientes de ese diálogo social es decir que tenemos los instrumentos pero no hay que olvidar que

es un tratamiento ajustado a su nivel competencial a su capacidad política para hacer cosas y no a planteamientos que están fuera

quien lo desee oportuno y puede plantear

de pensiones propio o que hagamos un modelo de relaciones laborales propio

en el aspecto declarativo es cierto que el micrófono lo aguanta todo y que cada uno puede decir lo que crea oportuno ahora no les da más que una forma

lo que uno quiere lo que pueden ser sus ensoñaciones o lo que pueden ser sus deseos aunque para nada tenga que ver con la realidad de lo que significa

europeos y la capacidad competencial y política que tiene este parlamento o que tiene el gobierno vasco o incluso que tiene congreso de los diputados o el gobierno de españa cada administración está trabajando en esos treinta y uno principios y derechos en la medida en que tiene competencias se está haciendo de manera progresista y progresiva cada vez se

y creo que en esa línea en la que nos podemos encontrar los socialistas digamos que en esta coyuntura política en un

a nivel de españa es cierto que tenemos recorrido porque nuestras pretensiones son muchas más de las que aparecen hoy consolidadas en nuestras disposiciones legislativas pero en ese trabajo estamos que en ese trabajo

primero en un gobierno de coalición en españa y después en una política de alianzas para sacar adelante los presupuestos y cantidad

lo hacemos también aquí en un gobierno de coalición en este escenario del país vasco sacando adelante la gobernabilidad del país y lo hacemos también en esta cámara

a los demás grupos que forman parte también de esta cámara aunque no formen parte del gobierno y bueno en esa línea vamos a seguir

adhesión unión a la carta social europea viene dada por nuestra condición nuestra capacidad y nuestras competencias y seguiremos avanzando y progresando

baitator y para contrastar lo que afirmo

una comparativa de la unión europea cuyas fuentes son eurostat y eustat de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno

atención sanitaria invalidez vejez supervivencia

desempleo vivienda y exclusión social no incluye educación

cantidad que en lo referente a la paridad en poder de compra creció

un dieciséis coma cincuenta y tres por ciento en términos porcentuales si no me fallan las cuentas y he traído suele ser habitual

el consiguiente gráfico en este mismo apartado que el eustat denomina cuenta de protección social hay un apartado de euros por habitante y que entre dos mil doce y dos mil diecinueve en este caso creció de siete mil quinientos cincuenta y nueve

un diecisiete coma noventa y ocho por ciento si atendemos a la tasa de riesgo de pobreza

euskadi está en lo más arriba lo que significa que estamos los que mejor que somos los que menos riesgo de pobreza tenemos en la unión europea con una evolución que varía a la baja desde el diecisiete coma siete por ciento de dos mil doce al trece coma nueve por ciento

este indicador sintetiza los resultados obtenidos de la medición tanto de pobreza en términos económicos pobreza económica

tengo más datos pero no voy a seguir con ellos porque no tengo tanta maña como algunos otros en sacar

no me lo digan le estoy escuchando señor urrutia no hace usted más

y me avise que tenemos el riesgo de morir de éxito ni autocomplacencia

básicamente porque creo que es un mérito compartido por los distintos niveles de administración

si bien es cierto que por el hecho de que así los he encontrado la evolución de los datos que he presentado viene dada desde dos mil doce año

y en honor a la verdad no deberíamos hacer ese ejercicio demagógico y falsario por el que cuando las cosas van bien el mérito es de la ciudadanía de los trabajadores y trabajadoras y de los distintos agentes implicados

sin quitar ningún mérito a nadie algo tendrán que ver en esta situación no exenta de claroscuros

como del actual y por eso hay que seguir con la marcha emprendida tomando como acicate esta carta social europea para desarrollar políticas sociales y profundizar en un desarrollo humano sostenible

de una sociedad más justa la marcha emprendida de un gobierno que presenta unos presupuestos en el que casi ocho de cada diez euros se dedican a departamentos sociales

la verdad es que por una parte me llamó la atención esta iniciativa porque desde el grupo que represento no la consideramos en absoluto necesaria desde el momento en que a dicha carta se adhirió

adhirió nuestro país ya en el año mil novecientos ochenta como también se ha dicho aquí en una segunda revisión el diecisiete de mayo

en el ámbito de la salud de la educación social el empleo de la protección social de la vivienda trata a la vez

concretos de proteger también a los colectivos más vulnerables como pueden ser las personas mayores

laboral como decía la fecha

elaboración de esta carta europea de derechos sociales en mil novecientos sesenta y uno fue ratificada por españa en mil novecientos ochenta y hay que decir que ya por ello

por lo tanto españa así y todas las comunidades autónomas que integran españa y españa en toda su extensión adopta el compromiso de la defensa y la promoción

fue revisada en mil novecientos noventa y seis y se introducen las reclamaciones colectivas y esta ratificación se realiza por españa también el diecisiete de mayo de mil novecientos veintiuno

y todos sabemos lo que es un tratado internacional quizás los juristas más pero por aproximación también cualquier persona puede saber y tener conocimiento de lo que es un tratado internacional que es un acuerdo internacional celebrado entre estados

como en este caso pueden ser las organizaciones internacionales u otro internacional que pueda gozar de capacidad para celebrar tratados internacionales en este sentido hay adheridos como he dicho aquí estados a este tratado internacional por eso decía que por estar ya adheridos es de aplicación es decir creo que esta

no añade nada es absolutamente redundante y en ese sentido

señala la constitución parte de nuestro ordenamiento jurídico los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en españa forman parte del ordenamiento jurídico por lo tanto no hace falta adherirnos a algo que ya está formando intrínsicamente parte de nuestro ordenamiento jurídico

bai esaten du que nos unimos a los principios de la carta social europea e insta al conjunto de las instituciones a seguir en el desarrollo de las políticas sociales pues sí también

decir que es innecesario que está muy bien traer estas iniciativas pero que

porque al final ya tenemos un ordenamiento jurídico que desde luego

la legislación y las disposiciones que se aplican en estas concretas materias

a lo establecido a los principios a las libertades que contempla

se hace imprescindible garantizar los derechos sociales ahora más que nunca es cuando los derechos sociales se alejan del ámbito de lo opcional para convertirse en una necesidad

y hoy las voy a hacer mías porque estamos viviendo unos momentos francamente difíciles que nos están retrotrayendo a la crisis del dos mil ocho por suerte

la manera en que esta vez se ha afrontado la crisis ha sido muy diferente

desde el gobierno y desde los ministerios de igualdad derechos sociales así como desde el ministerio de trabajo se ha antepuesto la protección social y laboral a cualquier otro tipo de interés

desde que unidas podemos llegó al gobierno y en particular desde que yolanda díaz asumió la cartera en el trabajo y economía social puso todo su empeño en su ratificación

para las personas y para la ciudadanía europea con independencia de su origen raza y defiende los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad

es el tratado más importante en cuanto a la protección de los derechos humanos sociales y aunque con veinticinco años de retraso desde nuestro grupo parlamentario nos alegramos de la ratificación que se llevó a cabo el diecisiete de mayo de este mismo año y también del refrendo del protocolo de reclamaciones colectivas tan importante como la carta pues sin este protocolo esta se hubiera quedado en papel mojado

de los derechos sociales la vinculación de la carta social reviste de una enorme importancia ya que nos permite abordar un debate fundamental en materia de protección social hasta qué punto el estado

la carta social europea con todos estos derechos es un tratado internacional vinculante

entre los que los estados pueden elegir qué derechos aceptan y cuáles no sin embargo la ratificación por parte del estado español ha sido completa y sin reservas

social al acoso sexual en el trabajo así como a la vivienda que ya se había dicho o a la igualdad de oportunidades

intentaremos que esta no se quede en el olvido que no sea uno u otro de tantos ejemplos de normas que solo sirven para escribir titulares y hacer debates frente a la galería pero que nunca acaban de aplicarse y si se aplican a golpe de sentencia o de tirón de orejas internacional en este marco con este horizonte desde el gobierno central y desde unidas podemos venimos impulsando medidas muy concretas en materia de derechos sociales como ya se han dicho la protección

la equiparación de permisos de maternidad y paternidad que poco a poco van calando y van propiciando cambios profundos en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y también de la sociedad vasca

por nuestra parte aquí en euskadi hemos defendido la plasmación de los derechos sociales en políticas públicas concretas valientes y transformadoras

unos u otros por conveniencias económicas o políticas desde elkarrekin podemos hemos traído a esta cámara por ejemplo la ponencia de cuidados la regulación de los precios de alquileres la ponencia de abusos sexuales frente a en la infancia el impulso de políticas que aborden

políticas contra el fraude laboral y contra el fraude fiscal no todas pero muchas de estas iniciativas no han tenido el respaldo de toda la cámara todas estas medidas y muchas más están en consonancia con lo que aquí hoy reclaman

como el grupo enmendante por un lado estamos a favor del impulso a nuevas medidas de protección social imprescindibles en el momento que nos está tocando vivir

por eso también vemos necesario el desarrollo de las medidas que ya están y no podemos caer en la complacencia que decían antes para concluir

es una expresión transnacional de solidaridad es la expresión más completa de reconocimiento de los derechos sociales es defender los derechos sociales de los más desfavorecidos es apoyar unas políticas dignas en materia laboral apoyar la carta social europea es avanzar en la inclusión y luchar contra las desigualdades y ahí en ese tipo de políticas desde elkarrekin podemos nos sumaremos siempre ya sea en el gobierno en las instituciones o en la calle besterik

beraz uste dut ekimena itzultzerakoan jartzen zuela asumir la carta social europea

eta asumir da atraer a sí tomar para sí hacerse cargo responsabilizarse de algo aceptarlo adquirir

de que se haga

adelante ni la reforma laboral que ustedes plantearon ni muchos de los elementos de la reforma laboral anterior que el partido socialista presentó

una adaptación de los preceptos de la carta a nuestra realidad me pueden explicar ustedes por qué se complementan aquí por ejemplo

yo creo que usted ha venido aprovechando

a hacer un emplazamiento a proseguir con la disputa

en quién es más nacionalista y eso lo expresa en su exposición de motivos es cierto que luego ha tenido una intervención y una réplica muy confusa y quizás por eso al final estamos confrontando pero en realidad usted viene a decir oiga nosotros somos vascos

creamos oportuno tenemos competencias para todo y aquí podemos establecer

interprofesional o lo que se nos ocurra a esto ha venido usted aquí

quizás no ha encontrado clima en la cámara para avanzar o profundizar sobre eso

a mí me parece oportuno aunque sea como gesto hablar de la carta social europea aquí a mí me parece oportuno hablar de esta

yo por lo menos me reconozco mucho más esta europa en la que ha sido capaz de ponerse de acuerdo por una circunstancia muy dramática como ha sido la pandemia para hacer políticas económicas y sociales diferentes y que por cierto

que son políticas de coyuntura y que por lo tanto dependerá de la acción política y del conjunto de la acción política

el que esta política de coyuntura se consolide se amplíe y se mejore yo quiero la nueva europa desde el punto de vista económico y social esta nueva europa de estos últimos meses de estos últimos dos años

hacia el futuro que se consolide y que mejore y esto efectivamente dependerá de la acción política y por lo tanto es bueno

una pérdida de tiempo o algo innecesario el que aquí se puedan plantear iniciativas de estas que

hay que ser un poquito más claro en el planteamiento y hay que ser un poco más concreto en el planteamiento

o de unirse a la carta social pues ya estamos adheridos y ya estamos unidos

porque quienes invocan el derecho a decidir pueden decir lo que les dé la gana y quienes invocan el derecho a la diferencia de los vascos pueden pensar que su forma de

y la pueden hacer al margen de pertenecer a un país que se llama españa o a una unión que se llama europea a una constitución o a unas competencias que se establecen en el estatuto de gernika bueno pues la pelea y es la pelea que

siempre que puede la saca y en este caso pues la ha sacado luego le ha quedado todo muy confuso muy difuso no ha sido capaz de hilar bien

ha sido en fin como una cosa excesivamente

una carta que se viene practicando hasta dónde se viene practicando hasta donde hoy conocemos con muchas políticas de carácter presupuestario económico y social incluso con el concurso de ustedes

es este el horizonte que queremos los socialistas no queremos más

otros lo querrán diferente pero es cierto que se viene actuando sobre los treinta y uno

bueno no se puede aquí hacer un planteamiento como si se estuviera incumpliendo la carta

de obligado cumplimiento para el conjunto de los países cuando se sabe que en materia económica política y social hay diferencias

aunque estén inspiradas por los mismos principios ya digo yo creo que ha hecho una cosa tan alambicada que

más que conseguir aguardiente ha conseguido solo agua gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

creo que he conocido bastante peores tiempos para la vida y en los últimos ocho o diez la verdad es que los considero bastante mejores y recordando

a aquella frase de ortega y gasset que hablaba de dos cosas memoria y esperanza

que abordar también el futuro aipatu duzu

que el tema indudablemente es de interés y podríamos hablar del momento actual que vive europa sus fortalezas sus debilidades y sería un debate sumamente

a la carta social europea cuando españa ya está adherida desde mil novecientos ochenta y luego posteriormente también se ha adherido con

y por lo tanto aplicamos los principios que en ella se recogen como no podía ser de otra forma eso es así gauzak kortajarena andrea

la señora kortajarena también hacía una referencia a la reforma laboral le tengo que recordar que ahora con esta disputa que hay en el

socialista y podemos europa ha sido muy clara es decir no quiere

laboral y por eso usted sabe muy bien que el propio señor sánchez ha cambiado su discurso y ya no habla de derogación de la reforma laboral por lo tanto tan mala la reforma laboral para el cumplimiento de los objetivos y de los fines que se supone que tiene un instrumento de tales características no ha debido de ser tan mala con la creación de quinientos mil puestos de trabajo

con una flexibilización de los mecanismos a las empresas para que puedan subsistir en escenarios de crisis con posibilidad de crear empleo con crecimientos del pib mucho más reducidos que antes de estar en vigor la reforma laboral o con

que tanto han servido a tantas personas pero que es un instrumento que ha sido posible gracias a que estaba incluido

egin daitekeela pero creo que señora

respeto a los derechos humanos a los derechos fundamentales y el primero es la vida
y en ese sentido he de recordarle que tienen una asignatura pendiente que es condenar el terrorismo de eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

un día como hoy a tener que defender en esta tribuna un tema como este que yo

que ya tenía que estar resuelto hace mucho tiempo sin embargo la realidad me obliga a pedirles una vez más un compromiso con la democracia

este tema se ha debatido ya en múltiples ocasiones en esta cámara el veintidós de febrero de dos mil dieciocho por ejemplo y la última el tres de octubre del dos mil diecinueve

de rechazo a los homenajes y recibimientos que se realizan a miembros de la organización terrorista eta cuando salen de prisión

es porque estos actos increíblemente se siguen celebrando

y humillación a las víctimas se sigue intentando reescribir la historia y se sigue intentando engañar a nuestros jóvenes

no estamos hablando de que esto ocurra o haya ocurrido en este tiempo una vez

el texto justificativo de la propia iniciativa que todos han podido ver hace una pequeña relación de alguno de los actos públicos realizados en las últimas semanas

se realizó en bilbao una concentración para rendir homenaje público a la etarra maite pérez

se colocó una pancarta en san sebastián homenajeando a los miembros de la banda terrorista eta rafael echeveste y maite pérez el dieciséis de agosto se colocó una pancarta en hernani felicitando al etarra gorka loran el dieciocho de agosto

en prisión y los huidos de la justicia el veintiuno de agosto se produjo un homenaje público con escenario ofrenda floral y aurresku de honor a tres miembros de eta en san sebastián el veintitrés de agosto en santutxu

con música banderas pasacalles y aplausos tal y como quedó reflejado en los medios de comunicación

esta iniciativa la han hecho necesaria los que siguen apoyando organizando y defendiendo estos actos

una vez más pero lo que no podemos hacer lo que no vamos a hacer nunca es callarnos y dejar de traer aquí y donde haga falta las veces que haga falta la denuncia alta y clara de estos comportamientos antidemocráticos y contrarios a los más básicos derechos humanos imaginen que un día abren el periódico y leen ustedes los siguientes titulares

o ana julia quesada sale de prisión aclamada por sesenta vecinos o un pasacalles de honor para el asesino de lardero se lo imaginan no verdad y en caso de que eso sucediese algún día se imaginan el sufrimiento añadido a la familia de diana quer del niño gabriel o de álex no estaría toda

es injusto que tengan que volver a soportar que parte de la sociedad aplauda homenajeé y reciba como héroes a los asesinos de sus familiares pues esto

sucede en nuestros pueblos en nuestras calles y en nuestras plazas

que se han publicado de verdad un pasacalles de honor para la terrorista de los nueve huérfanos

el etarra al que sortu ha recibido en bilbao con txistu e ikurriñas

sesenta personas aclaman a aitor fresnedo que ha cumplido veinticinco años por el asesinato de un policía nacional y otro más el asesino de treinta y nueve personas henri parot iba a recibir un homenaje el dieciocho de septiembre en mondragón

pero simbólico paso que se desconvocase la gran marcha inicialmente prevista pero como una parte de la sociedad vasca sigue pensando que matar estuvo bien y no puede ni siquiera ni quiere desvincularse de su pasado nos intentaron engañar con un cambio de por concentraciones en varios pueblos de euskadi y así de paso dificultaban el seguimiento a la policía

a la ciudadanía se le puede engañar hay que decirles que no que no nos engañan

porque lo hacen en los centros de los pueblos delante de las casas de las víctimas y porque buscan la máxima exposición posible no son

de abrazo a un preso que sale de la cárcel no son íntimos actos de celebración por la recuperación de un vecino o de un familiar tenemos ojos y oídos

se hacen convocatorias ocupando el espacio público se ondean ikurriñas se encienden bengalas se les entregan makilas se les hacen pasillos humanos

se tocan pasacalles se lanzan encendidos discursos políticos

a los asesinos a los que han matado por la espalda a los que no pensaban como ellos a los que han puesto bombas

un proyecto político a esta sociedad auténticos aquelarres de odio

que hace ya mucho tiempo que se encuentran fuera del tiempo en el que vive esta sociedad estos actos

y extorsionar a demócratas a ciudadanos inocentes

que siguen considerando que eta fue necesaria que siguen pensando que matar estuvo bien y que siguen pensando

eran héroes gudaris a los que esta sociedad debe estar agradecida honrar como héroes y tomar como modelos

que no se condene la violencia significa que una parte de la sociedad vasca sigue enferma enferma de odio de fanatismo y de violencia

que no admite ideas diferentes a las suyas que aplaude el uso de la violencia para conseguir fines políticos

es querer convertir a euskadi en un gueto de odio violencia e imposición totalitaria y esta no es la euskadi de hoy homenajear a asesinos a quién mataba por la espalda a quien ponían bombas

que necesita curar la enorme herida que le hizo eta

son la asignatura pendiente de la izquierda abertzale para convencer a la sociedad vasca

y por eso los demás tenemos la obligación moral cívica y ética de decir alto y claro que estas actitudes no son aceptables en una sociedad democrática que representan una intención totalitaria que lastra el progreso

de este pueblo y que no estamos dispuestos a permitirla porque no es de recibo

intentemos seguir blanqueando y justificando el terror y la violencia que haya quien sigue viviendo en la caverna del odio y del fanatismo y de la intransigencia

de la imposición y de la brutalidad contraria a los derechos humanos

seguir infringiendo daño y humillación a las víctimas del terrorismo cuando toda la sociedad les está pidiendo que recuperen la razón de una vez por todas y salga de la caverna

y la pregunta que inevitablemente nos surge es por qué no lo hacen

que los presos no son héroes sino delincuentes y asesinos y dos respuestas se me ocurren a

bildu tiene un problema grave con sus presos que siguen siendo parte esencial de su cultura de su pasado y de su identidad y a pesar de los enormes costes políticos que para bildu tiene

defendiendo lo indefendible tiene miedo a las peores consecuencias que tendría un resquebrajamiento del apoyo de estos colectivos lo cual pone de manifiesto las debilidades estructurales de esta formación política cuyos principales puntos débiles están más dentro que fuera de ella

como se hacen estos actos del pasado de la violencia de eta de la defensa de los terroristas es que esta postura en el fondo está aquejada de una enorme debilidad

pero ya va siendo hora de hacernos mayores de madurar de asumir la responsabilidad de lo que se hizo

porque más vale tarde que nunca y mientras tanto ayer hoy y mañana

cada vez que un terrorista sale a la calle volverán a lo mejor en frente de la casa de sus víctimas

a encender las bengalas y a hondear las ikurriñas mientras le entregan ramos de flores y le felicitan por matar bien

un poco somos todos por permitirlo pero en primer lugar las autoridades que teniendo instrumentos legales suficientes

y también los legisladores por no ser capaces de dar una cobertura legal de mejor calidad

y especialmente somos nosotros incapaces de ponernos de acuerdo

buscando las diferencias entre los partidos y haciendo una política pequeña de bajo vuelo

y que esto esté ocurriendo tiene consecuencias mucho más graves y mucho más profundas de lo que aparenta en primer lugar porque está dificultando y retrasando la recuperación de la normalidad

que quedó profundamente herida y traumatizada por la actividad terrorista de eta

un mensaje tremendamente pernicioso que matar estuvo bien si se hizo para imponer una ideología

son los héroes a los que deben emular y esto generará violencia en el futuro sin duda pero no podemos analizar este asunto correctamente

que los ha defendido y que los sigue defendiendo en este parlamento y en cada uno de los ayuntamientos en los que ha podido hacerlo y que se niega a condenar la violencia terrorista

y mientras tanto está desacreditándose ante la sociedad vasca perdiendo apoyos incluso internos e hipotecando su futuro de forma grave nada ni nadie trabaja más en contra de bildu que ellos mismos manteniendo esa actitud

un déficit democrático importante porque un partido actual no puede defender la violencia como instrumento para fines políticos y cuando no la condenan

lo están haciendo miren señores de bildu

sino más bien como una oportunidad hoy tienen una nueva oportunidad para desmarcarse de toda esta porquería

basta con votar afirmativamente pero me temo que ni siquiera podemos esperar todavía de ustedes una abstención

cada vez son más las voces que reclaman un cambio al respecto que en la intimidad confiesan que no pueden admitir que matar estuvo bien que fue un error y un fracaso

que la historia reconocerá como un gran aporte a su propio partido pero tampoco olvidemos la postura de los partidos que apoyan al gobierno lamentablemente hoy no va a poder salir de esta cámara un acuerdo como ya ocurrió anteriormente de todos los partidos excepto bildu

por dos razones por una parte por su negativa a firmar nada con vox ni siquiera

y que me parece muy poco democrática y especialmente cuando ustedes no tienen ningún escrúpulo

y por otra parte tampoco entiendo su actitud un tanto inamovible en este tema

y sin asumir ninguna responsabilidad al respecto no me parece de recibo pero no puedo ni quiero terminar esta intervención sin acordarme de las víctimas

porque nadie ha pagado tanto por ella ellos sí que nos han dado un ejemplo de dignidad de madurez y de democracia que nunca les reconoceremos suficientemente

gracias por tanto gracias por todo ellos sí que merecen pasillos de honor ramos de flores homenajes y fuegos artificiales

buenos días señorías efectivamente en vox rechazamos y condenamos rotundamente los homenajes a etarras y cualquier acto de exaltación conmemoración o recuerdo de aquellos asesinos que tanto dolor han causado

efectivamente es una reclamación que en este parlamento se ha traído ya en repetidas ocasiones la última vez quiero recordar que fue el quince de octubre del dos mil veinte

por cierto nadie participó a excepción del pp

debaten en fin muy democrático ahora vuelve a ser debatida en esta cámara a traerla en el orden del día el grupo popular ciudadanos y como digo ahora sí debaten cuando se trae el tema de los deleznables ongi etorris en tantas ocasiones es porque

sigue siendo habitual en nuestras calles y esto es algo que no debemos permitir si queremos una democracia sana

desde vox tenemos claro que el diagnóstico de este problema lo tenemos sabemos dónde está pero se debe de atajar con contundencia con firmeza ustedes se desviven por la legalidad siempre la tienen en cuenta cosa que está muy bien y nosotros también defendemos pero se olvidan del orden ley y orden

por qué no la aplicamos y cortamos de raíz este insulto a las víctimas es más la transaccional que hoy nos traen pnv pse y podemos prácticamente es una copia de lo aprobado en el dos mil diecinueve

qué curioso debemos terminar con estos homenajes a etarras y todas aquellas iniciativas similares porque solo tienen un único fin blanquear la historia criminal de eta los agravios a las víctimas del terrorismo no están solo en los homenajes los vemos cada día en nuestros pueblos en nuestras ciudades pintadas que permanecen meses en nuestros muros

grafitis con las caras de asesinos quién es el responsable de que todo esto perdure tanto en el tiempo por qué gobierno vasco y ayuntamientos no hacen nada

se logre evitar la convocatoria de estos homenajes tan vergonzosos este parlamento debe proteger de una vez por todas el honor y la memoria de las víctimas del terrorismo de eta insistimos nuevamente en la necesidad de que nuestra ertzaintza

también creemos necesario una modificación de la actual legislación para poder prohibir estos actos que permita actuar penalmente contra aquellos que organicen y convoquen homenajes contra este tipo de personas una legislación que otorgue a las autoridades vascas y a la policía necesarias para impedir prevenir y o castigar a aquellos individuos que pretendan seguir burlándose de las víctimas memoria dignidad verdad y justicia estas palabras tan utilizadas por la señora artolazabal que además hoy está aquí presente

y sigan siendo un insulto a las víctimas tanto pedir es

en el país vasco estamos hablando leyendo escuchando incluso viendo algunas películas

los años del terrorismo en euskadi sobre los años de la violencia política en euskadi sobre los años de las vulneraciones de los derechos humanos en euskadi y sobre todo también de las consecuencias de esas violencias y sobre todo también poniendo el foco en donde pensamos que tiene que estar que es en las víctimas

zitzaion omenaldi publiko bat desde la primera movilización

de euskadi a los movimientos católicos de base

a la violencia política viniera de donde viniera y es bueno creemos y pensamos que es bueno

en euskadi y sobre todo es bueno escuchar escuchar a quien es diferente escuchar testimonios de víctimas de todo tipo pero también a la sociedad en general y también a personas que cometieron graves vulneraciones de los derechos humanos y que en un paso en un gesto

del daño causado en un compromiso claro de reconciliación y de compromiso con la deslegitimación de la violencia hace unas semanas escribía edurne portela que seguramente iba a ser imposible

unívoco sobre nuestro pasado pero que sí que era necesario concretar un mínimo de verdad compartida entre todos y entre todas y esa verdad

pasa por la deslegitimación absoluta de todas las violencias en democracia eta hori da gure

entre la política y la ética como si ambas fueran categorías pertenecientes a mundos separados como si los objetivos políticos o las razones de estado

ético como si el crimen se autojustificara al perpetuarse en nombre de un ideal

de estado hoy de nuevo creo que tendría que ser un consenso entre todos los grupos que ninguna meta política ninguna justifica ninguna

hoy hemos venido a hablar de una iniciativa del partido popular ciudadanos sobre los llamados ongietorris desde nuestra opinión los ongietorris que si se realizan como un ámbito de exaltación son un ejemplo claro de heridas abiertas que no terminan de cerrarse en este país y en ello tenemos una exigencia muy clara que se dejen de hacer

público que la voluntad política que hemos escuchado en las últimas años y en las últimas semanas por parte de la izquierda abertzale pensamos que también sea sincera y pensamos que el camino sea

no se vuelvan a realizar homenajes a personas que han cometido graves vulneraciones de los derechos humanos y esa mano

pensamos que es el camino y ese va a ser también nuestro nivel nuestra petición y nuestra

de cara al futuro sinceramente digo que pensamos que ese sea el camino ese camino por ejemplo el consenso también que tenemos hoy el consenso de la legislatura pasada y también otros consensos trabajados en el marco por ejemplo del foro social por muchos de los partidos políticos que estamos en esta cámara creemos que ese es el camino elkarrekin podemos izquierda unida tenemos muy claro que una cosa es alegrarse

de prisión que eso es una situación una reivindicación muy clara que hacemos en nuestra enmienda

que tienen el derecho de acoger a estas personas que han cumplido además su pena pero también al mismo tiempo proponemos y de forma muy clara que

exaltación y se realicen desprovistos de los elementos que puedan suponer una

la memoria y el momento concreto de las víctimas

de división y una dificultad añadida para la construcción

dando muchos pasos en euskadi y también lo hacemos desde la defensa del derecho a una segunda oportunidad para todas las personas que tienen al salir de

ni con la policía ni con el código penal está con la construcción de consensos con la construcción de imperativos éticos que nos tienen que obligar a todos y a todas sobre todo con una visión muy clara de que las víctimas tienen que estar de todas las vulneraciones de los derechos humanos tienen que estar en el centro de la acción política y de la acción pública y de la acción política de todos los grupos parlamentarios y todos los grupos de esta cámara

sobre un asunto que hemos discutido muchísimas veces en esta cámara y sobre la que mi grupo no tiene

a debatir o al contrario pero sí quizá añadir algún elemento

los socialistas no nos vamos a cansar nunca de denunciar los homenajes a terroristas recién salidos de la cárcel que consideramos absolutamente inaceptables desde todo punto de vista

la excarcelación de los asesinos de sus familiares suponen una doble victimización porque a la violencia física que sufrieron en su momento

por la espalda pero son también una humillación para el conjunto de la sociedad vasca porque una sociedad que se considera sana y decente no puede permitir no debe permitir el homenaje público y festivo de unos asesinos como si fueran un referente porque estos recibimientos kalejiras montajes de todo tipo que hemos visto en los últimos tiempos lo que hacen es elevar al terrorista a la condición de héroe

que es un ejemplo a seguir y que su causa fue justa

de ser y eso precisamente eso no lo podemos admitir lo hemos dicho muchas veces y ahí nos van a encontrar señor gil vegas claro que sí nos van a encontrar en la condena y el rechazo

nos van a encontrar en la defensa de las víctimas en la búsqueda de reconocimiento verdad y reparación para esas víctimas nos van a encontrar

encaminadas a la deslegitimación de la violencia y a la promoción de valores éticos y democráticos entre la ciudadanía sobre todo entre los jóvenes de euskadi

en la exigencia firme al mundo abertzale para que acabe con esos homenajes nos van a encontrar siempre a los socialistas donde no nos van a encontrar como usted comprenderá es en las estrategias que vienen dadas desde madrid para tratar de desgastar

porque eso y no otra cosa es la petición de cese del delegado del gobierno que ustedes han incorporado

que ya han presentado por cierto también en el congreso de los diputados

porque usted sabe y esto se ha discutido aquí ya muchas veces que el gobierno no puede por sí mismo esos actos y son conscientes perfectamente conscientes de ello se ha dicho ya la ley de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo prohíbe los actos de enaltecimiento del terrorismo y usted sabe que tanto el delegado del gobierno como las fuerzas de seguridad la ertzaintza la policía nacional la guardia civil

que están en su mano para evitar que se desarrollen actos que supongan enaltecimiento del terrorismo que cuando el delegado del gobierno tiene conocimiento de la organización de un ongi etorri

ejercer alguna acción penal o solicitar su prohibición usted sabe que cuando el acto lo organiza un ayuntamiento la delegación interpone el correspondiente recurso contencioso

pero que cuando lo hace un particular la cosa es más complicada porque la vía penal no contempla esta cuestión y esos recursos no están prosperando y lo hace

años porque si el artículo quinientos setenta y ocho del código penal tipifica el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas lo tipifica pero la jurisprudencia establecida por el tribunal constitucional el parlamento europeo y el consejo exigen que esas acciones entrañen riesgo real para las personas o para el sistema

que desde el dos mil diecisiete la audiencia nacional viene considerando que cuando se trata de organizaciones no activas como es el caso de eta no existe ese riesgo y en consecuencia procede archivar esas denuncias y el último ejemplo lo tuvimos este pasado mes de septiembre con la marcha

usted sabe todo eso porque eso ya ocurría cuando gobernaba el partido popular y los delegados del gobierno de su partido se hartaron a explorar esa vía penal

iniciativa y supondrá que entre mis tareas inmediatas para después del congreso del partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra

el cese de mi compañero denis itxaso al que por cierto le tengo mucho aprecio pero sobre todo porque creo que está haciendo un magnífico trabajo y en el caso que hoy nos ocupa está cumpliendo escrupulosamente con la ley que es lo que le corresponde a un estado

nos quedamos quietos en absoluto por un lado el gobierno de españa ya está trabajando en una modificación de la ley de víctimas del terrorismo para dotarse de instrumentos con los que combatir estos actos cosa que por cierto el partido popular no hizo en los siete años en los que estuvo en el gobierno y por otro lado está lo que apuntamos

de la iniciativa que presentamos el grupo nacionalista y nosotros como enmienda a su

a que dejen de hacerlo y apelamos a todos los partidos absolutamente a todos los partidos instituciones y agentes sociales a promover activamente entre la ciudadanía la

cuyo recorrido ya conocemos y otra la que nos corresponde a los partidos políticos la que podemos trabajar aquí la que está en nuestras manos otra cosa lo que desde aquí podemos aportar el apoyo y acompañamiento de las víctimas que también

de los partidos que aquí estamos representados en el camino de la memoria en la construcción de una convivencia democrática porque como le he dicho al principio

aunque sean menos dicho sea de paso es de todo punto

porque con eso no gana absolutamente nadie al contrario perdemos todos como sociedad y a todos nos corresponde

de la izquierda abertzale poner fin a todo esto y acabar con la locura

se justifiquen historias de crímenes y de terror

ante ustedes muchas veces y la cuestión es que lo saben y lo han dicho ya hace tres semanas en aiete usted mismo señor

en la medida de sus posibilidades el sufrimiento causado a las víctimas de eta a según sus propias palabras aliviarlo desde el respeto la consideración y la memoria

sinceras sus declaraciones aquí tienen un primer daño que mitigar aquí tienen una primera herida que sigue sangrando y que les corresponde a ustedes hacer que cicatrice porque de nada sirve decir que se siente el dolor de las víctimas

sucedido mientras se homenajea al responsable de que sucediera porque en el fondo rendir tributo

no es sino otra forma de legitimar el terrorismo y porque si de verdad sienten el dolor de las víctimas lo mínimo que se les puede pedir lo mínimo

en la vía pública y entre aplausos de sus vecinos hauxe da

hori benetan sinestea eta aldarrikatzea nahikoa da y por tanto no me voy a extender más lo hemos dicho muchas veces y en este parlamento también son tres principios básicos en una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos uno

de estado no es aceptable es injusto y está mal

y lo estuvo también antes dos todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen los mismos derechos a la verdad la justicia y la reparación

todas las víctimas todas las víctimas merecen nuestro respeto y consideración y debemos evitar cualquier acto que aumente su sufrimiento desgraciadamente

algo que es tan básico sigue siendo imposible que este parlamento lo proclame por unanimidad

no somos todos los responsables de esto esto no es algo que se reparte a prorrateo los responsables

quienes justifican quienes defienden o quienes callan ante estos homenajes no somos todos estos homenajes han sucedido también lo ha dicho el señor

con gobiernos del pp y con otros delegados del gobierno y sí señor gil los derechos fundamentales son para todas las personas y el derecho a la libertad de expresión el derecho de manifestación son derechos fundamentales que los

vienen protegiendo una y otra vez bien

y sin embargo a pesar de las palabras de comprensión del dolor de compromiso para mitigar el sufrimiento de las víctimas demostrar empatía todo está supeditado a los hechos

tienen que pasar para que podamos pasar esta página nuestro compromiso con estos principios ha sido claro en el pasado lo es ahora y lo será también en el futuro porque son básicos para construir una sociedad plenamente democrática y decente y asumirlos es condición necesaria

yo mismo señorías me encuentro en este momento a la espera del segundo juicio por el caso bateragune doce años después de mi detención

la pena de seis años que se nos impuso por qué y por haber impulsado

por vías exclusivamente pacíficas y democráticas dictaminado el tribunal europeo de derechos humanos

espetxe zigor bakar bat ere ordaindu billy el niño y el resto de los más de cien miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado implicados en acciones de guerra sucia o torturas y condecorados por los servicios prestados

ostentación pública y política de sus medallas de sus ascensos y pensiones en algunos casos vitalicias sus partidos

continúan minimizando cuando no negando realidades

humillando y revictimizando a sus miles de víctimas de hecho su partido

de coalición el partido popular continúan enalteciendo el franquismo e impidiendo todo avance en materia de memoria democrática dedicando calles al golpista millán astray o al carnicero de sevilla queipo de llano

de las miles de familias que aún tienen a los suyos en las cunetas su partido

y el partido popular continúan ensalzando a la guardia civil cada doce de octubre un cuerpo militar al que el informe sobre la tortura al que me he referido antes atribuye nada más y nada menos

casos de tortura y el estado el estado español

imponiendo la unidad de españa por encima de la voluntad democrática de vascos y catalanes tal y como pudimos comprobar el uno de octubre

señores de ciudadanos y del partido popular ustedes no pretenden

y la convivencia porque si así fuera cargarían en primer lugar y antes que nada contra todas esas realidades esas sí lacerantes sangrantes y humillantes desde todo punto de vista

usted ustedes no pretenden la construcción de la paz y la convivencia no porque si así fuera no continuarían manipulando forzando

como lo hacen y desde luego no traerían a esta cámara propuestas criminalizadoras propuestas que lo que buscan es continuar llenando las cárceles cuando de lo que se trata es precisamente de vaciarlas

ustedes saben a estas alturas perfectamente que los ongi etorri no son actos de homenaje ni mucho menos de enaltecimiento

celebración y expresión de alegría por la excarcelación de personas queridas que no cabe olvidarlo han cumplido íntegramente sus penas y que también conviene recordar han hecho una apuesta inequívoca por las vías pacíficas y democráticas contribuyendo de forma determinante a la desaparición de la violencia de eta así pues son por así decirlo

de esas personas en su entorno familiar objetivo declarado por cierto de la legislación penitenciaria en vigor bestalde badakizue ongi jakin ere

si lo han tenido ha sido porque hay quien interesadamente se ha encargado de ello

y en explotarlos mediáticamente con fines que todos conocemos ppko jaun andreak

errelato bat justuena eta injustuena un relato que poco tiene que ver con lo que ha pasado en este pueblo y un relato sobre el que desde luego

estable y duradera buscan hacer creer ustedes que en este pueblo no ha existido conflicto político

y miles de torturados por el estado son fruto de nuestra imaginación que la única violencia ha sido la de eta y que las únicas víctimas dignas de tal consideración

señor barrio aquí no solo ha existido la violencia de eta aquí ha habido múltiples y múltiples responsabilidades aquí ha habido guerra sucia y terrorismo de estado aquí se ha torturado a miles y miles de personas aquí se ha tirado a matar

y se han ilegalizado partidos políticos aquí se ha encarcelado a la gente por sus ideas continúa habiendo enterrados en las cunetas miles de personas ppko eta ciudadanoseko jaun andreak bakeak eta elkarbizitzak

hagan aquello que ya viene haciendo el independentismo de izquierda asumir su parte de responsabilidad sobre las violencias y sufrimientos habidos en este pueblo

comprometerse activamente con el que ha de ser el principio rector de este nuevo ciclo todos los derechos para todas las personas desde el derecho a la vida qué duda cabe hasta el derecho a la libre determinación de los pueblos termino

y de ciudadanos ustedes pretenden seguir cavando trincheras nosotros queremos levantar puentes ustedes están en la batalla del relato nosotras

por ello no vamos a secundar su iniciativa no vamos a contribuir lo más mínimo a alimentar su agenda y por ello también llamamos al resto de grupos a que tampoco lo hagan por responsabilidad en su lugar vamos a hacer algo

importante y gratificante vamos a continuar avanzando en el camino emprendido hace diez años vamos a seguir profundizando en los compromisos

no tenga la menor duda si algo demuestra esa declaración

es que al independentismo de izquierda no le resultan ajenas aquellas solicitudes

honestos y sobre todo de forma privada le son realizadas yo les puedo asegurar que de aquí en adelante y en relación a este asunto

gracias señora presidenta señor andueza

que pedir algo tan básico como que dejen de celebrarse recibimientos públicos a terroristas es una estrategia contra sánchez

muy elemental y muy básico y yo creo que es mezclar un poquito las cosas no mire me parece que usted

para recuperar la dignidad de la sociedad vasca no tiene nada que ver con

y me preocupa que se sienta interpelado claro mire respecto al delegado del gobierno

y que realmente le estamos pidiendo que lo haga que se moje un poco más algo más que solicitar información a la ertzaintza cuando haya una cosa de estas es decir creemos que hay más cosas que puede hacer pero en fin

de su intervención no sé exactamente por dónde empezar porque lo que ha dejado es muy de manifiesto muy claro dónde están ustedes y están ustedes en una situación

muy distinto al del resto de la sociedad habla usted de política penitenciaria criminal e ilegal mire vivimos en un estado de derecho lo que sí que era profundamente

era matar gente eso sí que es profundamente criminal e ilegal ha quedado evidente que siguen ustedes defendiendo a los presos

y ha quedado también evidente en su intervención que ustedes apoyan los ongi etorris

y esto les señala su propia responsabilidad pero para que quede claro nosotros condenamos todos los terrorismos para que eso no les sirva como excusa mire ayer mismo por la tarde noche

asociación que ha surgido en euskadi que se llama en latín no en euskera en la que

y de memoria y el historiador

el noventa y dos por ciento de las víctimas del terrorismo son de eta el noventa y dos por ciento el noventa y cinco por ciento

se produjeron después de la muerte de franco no nos cuenten la película otra vez de que aquí había dos bandos de que aquí había una guerra porque esto ya no se lo cree nadie esto ya resulta

y el problema es que hemos reconocido a las víctimas y hay que hacerlo incansablemente pero la realidad es que después de las víctimas que fueron las directas la víctima del terrorismo fue toda la sociedad vasca bien

vamos a apoyar la transacción que ustedes señores del pnv y del soe han firmado con podemos porque es la misma

y además la compartimos por qué no la hemos firmado nosotros nos hubiera gustado dar un paso más por una razón evidente

se siguen produciendo luego por lo tanto parece evidente que no es suficiente por eso pensamos que es mejor que defendamos defender la nuestra

aquí una unanimidad al respecto pero repito que la unanimidad

que hemos intentado negociar todo lo posible y que el señor

para alcanzar este objetivo en fin nada más que decir que esperemos que sea la última vez que tengamos que repetir este debate en esta cámara gracias

gracias a que la sensatez va creciendo entre la ciudadanía la presencia de vox es cada vez mayor y la de podemos cada vez menor señor martínez ustedes

la razón de que hoy no haya acuerdo para rechazar los homenajes a asesinos en serie para avanzar hacia su prohibición no es de vox y ustedes lo saben

unidad en la firma hoy sí sí ustedes son cómplices de bildu en este debate y eso lo que hace es reflejar un insulto a las víctimas repito la responsabilidad es suya saben

les dejan utilizar espacios públicos para insultar a quienes aún padecen las consecuencias del terrorismo que herri batasuna y sucedáneos animaron aplaudieron y siguen haciéndolo

que son quienes sostienen los homenajes de la infamia esos sí que son demócratas verdad señores comunistas

en la casa de la propaganda y la mentira ayer vox este partido que tanto les molesta estuvo con las víctimas y no en una fotografía al lado de los señores de bildu y les voy a trasladar literalmente lo que nos dijo una víctima de eta creo que es algo que hay que traer a esta cámara les hablo de antonio salvá

la última víctima mortal de la banda criminal eta

me dijo con muchísima más legitimidad además de la que puedan tener cualquiera de ustedes o incluso de mí cada homenaje es como si abrieran otra vez la tumba de mi hijo el etarra de turno disparara otra vez a los restos

escupieran a esos mismos restos esto me lo dijo ayer comiendo

a la lucha de la gente que nos precedió usted puede estar sentada

creo que el debate hay que enfocarlo en este sentido como estamos viendo en la sociedad creo que la imagen que estamos dando

no es la mejor de este parlamento creo que tenemos que aprender mucho de las víctimas que están haciendo un esfuerzo muy importante también con la reconciliación con la paz y también con muchas personas con muchos victimarios que también están dando pasos

me gustaría dejar eso encima de la mesa por desgracia en euskadi tenemos muchas víctimas

de eta y luego se han relatado muchísimas víctimas de aparatos parapoliciales del propio estado torturados de otros grupos terroristas tenemos muchas por desgracia y creo que esa es la base aunque no sea un tema cuantitativo sino cualitativo ese tener tantas personas

de cierres de periódicos de tantas y tantas vulneraciones que han pasado en este país creo que eso debería ser la base para que todos los grupos políticos que estamos en esta cámara nos mirásemos a la cara y

que ya tenemos en materia de memoria

deslegitimar la violencia que no haya un solo homenaje a ninguna persona presa que haya cometido una vulneración de los derechos

también del estado todas y cada una de las vulneraciones de los derechos humanos que se hayan podido hacer en su nombre esa creo que tiene que ser la base del futuro

también a las nuevas generaciones ese curar heridas mirar hacia adelante y construir una convivencia

vuelva a pensar que matar pueda ser una herramienta para construir una alternativa política o defender una razón de estado

estas cuestiones no se hace presentando iniciativas de forma unilateral se hace trabajando continuo con mucho trabajo de cocina

en esta transacción hacia los acuerdos que podamos afirmar todos y ni siquiera una pnl es lo más importante lo más importante es lo que se haga luego en la calle

eskerrik asko mahaiburu andrea mire señor gil vegas usted no puede negar

esta iniciativa a esta cámara para atacar al gobierno y que eso forma parte de una estrategia que está perfectamente coordinada y que lo han presentado en todas las cámaras y es imposible

evidentes y porque han sido precisamente ustedes los que han incorporado en esa iniciativa de origen la solicitud

del delegado del gobierno dígame usted si eso no es un intento de atacar y desgastar al gobierno no niegue lo evidente mire desde dos mil diecinueve

que ustedes se han desmarcado del consenso que ustedes no han querido seguir manteniéndose en ese consenso tendrán que explicar por qué probablemente y en parte lo ha reconocido porque su deseo estaba más en pactar con la extrema derecha que con los partidos democráticos que sí nos hemos mantenido firmes

qué ha cambiado que ya no gobiernan ustedes que ya no gobierna el partido popular que ahora gobierna el partido socialista y eso es algo que ustedes no lo soportan y tercero

que cuando ustedes gobernaban y los datos están ahí y los datos están por tanto quizá los que tengan que dar explicaciones sean ustedes nosotros señor rodriguez creo que le ha fallado un poquito la memoria le ha fallado un poquito la

usted ha hablado de muchas cuestiones que están sin resolver que efectivamente es cierto que están sin resolver hay crímenes que están sin resolver hay casos de tortura que están sin resolver que se han tratado

de cuyos informes y de cuyas comisiones también hemos participado en los socialistas vascos

y que quizá tampoco estaría de más que algunos de los suyos

de esos crímenes que están sin resolver que evidentemente a los socialistas vascos siempre siempre siempre siempre

de la verdad para todas las víctimas en el esclarecimiento de esos asesinatos

y por supuesto también en el reconocimiento de esas víctimas por algo fue un gobierno socialista fue la vicelehendakari idoia mendia quien aprobó

para reconocer a las víctimas de abusos policiales y fuimos nosotros los socialistas y siempre estaremos en eso en la condena

de todas las violencias no solo de algunas de todas las violencias y en el esclarecimiento y solicitud de verdad para esas víctimas que todavía lo están

nos ha traído aquí un glosario de cuestiones que están sin resolver y también de cuestiones que han ocurrido en este país y la memoria le ha fallado porque le ha faltado reconocer que en este país se ha asesinado se ha secuestrado se ha extorsionado se ha amenazado por el mero hecho de pensar diferente a ustedes y esa parte es fundamental porque es precisamente la que le interpela

de la que se ha olvidado mire no se puede pretender avanzar haciendo un relato de parte es imposible porque entonces la convivencia

construir de cara al futuro será una convivencia que tenga muchas carencias serias carencias y este camino lo tenemos que recorrer todos sin excepción

no se puede avanzar cuando ustedes no asumen lo que le corresponde

se ratifique con hechos y que efectivamente cuestiones como los ongi etorris y otras tantas que creo que no se deben devolver a producir entre otras cosas el reconocimiento

en este país también venga de su mano y no solo de la mano de los que siempre hemos defendido

y que tiene usted buenas intenciones y las ha tenido durante estos días

a diferencia de usted su propuesta no su propuesta no traía buenas intenciones

con su propuesta y con su actitud lo que hacemos es desandar caminos ya andados en este parlamento pero bueno pues usted sabrá por qué lo ha hecho en todo caso nosotros seguimos manteniéndonos en esos principios básicos que estaban ya

en el año dos mil diecinueve que hemos traído en nuestra enmienda y que yo he intentado resumir y no alargar en mi primera intervención espero que podamos encontrarnos cada vez más rodriguez jauna

no se trata de que ustedes condenen toda forma de violencia toda forma de terrorismo

absolutamente nada la clase política está para resolver los problemas de lo que se trata

ustedes asuman su responsabilidad en esas violencias y sufrimientos de las que hemos hablado porque qué duda cabe que la tienen

no se trata de condenar sino de asumir la responsabilidad de cada quien que es lo que ya viene haciendo el independentismo de la izquierda de asumir esa responsabilidad pero sobre todo

de comprometerse activamente con ese principio al que me he referido antes y que ha de regir este nuevo ciclo este nuevo tiempo en nuestro país que no es otro que el compromiso activo con todos los derechos para todas las personas lo he dicho desde el derecho a la vida qué duda cabe por supuesto hasta el derecho determinación de este pueblo porque no cabe obviar no cabe pasar por alto que en definitiva

irresuelto al que tan solo cabe dar respuesta y solución de forma democrática dando la voz y la palabra al pueblo vasco

mientras que los militantes de eta y aquellos que sin ser militantes de eta hemos tenido que permanecer largos años en la cárcel de forma en mi caso

han pagado o hemos pagado digamos por nuestras responsabilidades cuánto han pagado los responsables de la violencia del estado

los genocidas franquistas cuánto han pagado los criminales de la guerra sucia

los responsables de las miles y miles

cero cero y dicho sea de paso y entiendo que esto habla muy bien de las víctimas de esa violencia del estado nadie está pidiendo nadie desea que esos responsables tengan que entrar a la cárcel no se trata de eso

no podemos pasar por alto que todas esas personas que no son unas pocas como sugería

estamos hablando de cerca de cuatrocientos asesinados por el estado y de miles y miles de torturados qué duda cabe que esas personas tienen derecho a la verdad

que las víctimas de eta pero continuar negándose a asumir esa responsabilidad hacer lo que parece que va a hacer ahora su partido en madrid que es alargar el levantamiento de los secretos oficiales nada más y nada menos que a cincuenta años eso va

a esa búsqueda de la justicia la verdad y la reparación para todas las víctimas bukatzeko esan dut nire lehen interbentzioan guk